dituela esta ley es la expresión formal documental en términos financieros y contables del conjunto integrado de decisiones

de la actividad económica realizada por la comunidad autónoma de euskadi y con ello no solo incorpora un por menor de gastos e ingresos sino un cúmulo de mandatos regulaciones y maneras de entender la economía de lo público en el año presente me atrevería a decir que este ejercicio lo hace además

de un proyecto que desde las propias directrices de confección aprobadas en junio pasado bascula entre novedades en materias transversales como la igualdad

más sectorialmente clásicas también a estas alturas conocen el acuerdo al que el gobierno ha llegado con el grupo parlamentario de elkarrekin podemos para sacar adelante las cuentas y de cuyo contenido daré cuenta pormenorizada más adelante

el contexto económico que vive euskadi el marco presupuestario que se ha tenido en cuenta para priorizar las políticas públicas a desarrollar en dos mil veinte

que aprueba los créditos como saben el proyecto de presupuestos generales de euskadi para dos mil veinte

el presupuesto global es diez millónes de euros inferior al proyecto

a la menor necesidad de amortización de la deuda pública sin embargo el presupuesto operativo es decir el disponible para gasto en políticas públicas aislando los activos financieros

es decir un dos coma nueve por ciento más que el del año pasado

orientación estratégica a través de su inserción en un horizonte a medio plazo y su vinculación con los objetivos de los principales planes estratégicos y departamentales

el proyecto presupuestario para dos mil veinte sin olvidar lo anterior se caracteriza ya desde las propias directrices por su enfoque de género y el importante esfuerzo económico en la acción contra el cambio climático y la sostenibilidad coherente con la declaración

se trata de un proyecto de presupuestos que se formula en un contexto de crecimiento de la economía vasca significativamente mayor que el de la zona euro que es del uno coma dos por ciento

sin mirar al de españa que es el de un dos por ciento un marco económico que ha recibido el aval

al considerarlo prudente y en un escenario de confianza y que prevé un incremento

en ambos años la demanda interna será el motor de la economía con una aportación del saldo exterior que será ligeramente negativa

perderán algo de intensidad a medida que transcurran los trimestres por otro lado la industria irá superando las dificultades actuales pero sin recuperar el intenso ritmo de los años anteriores

seguirán creciendo por encima de la media la guerra comercial los conflictos políticos

entre otras razones han creado inestabilidad pero el deterioro de la economía global limitado es cierto que los ritmos de avance de las principales economías mundiales se han visto ralentizados pero por el momento se descarta un frenazo brusco y generalizado la unión europea mantiene su actividad económica relativamente estable y la economía española

las previsiones reflejan un incremento del empleo en euskadi de uno coma seis por ciento para este año y del uno coma dos por ciento para el año que viene es decir quince mil trescientos empleos más este año

el año que viene como ven se ha superado el objetivo de legislatura de reducir al diez por ciento la tasa de paro siendo nuestras previsiones del nueve coma nueve como media para este año

bi mila hamazazpitik en lo referente a los ingresos las aportaciones de las diputaciones forales presentan un incremento de trescientos dieciocho millónes de euros

millónes lo que supone que el ochenta y nueve por ciento del presupuesto total

precisamente la buena situación de las cuentas vascas ha permitido acometer como saben inversiones financieramente sostenibles por valor de cincuenta y cuatro coma cuatro millónes en dos mil dieciocho

como ya he señalado en múltiples ocasiones la regla de gasto limita de manera incómoda la posibilidad de destinar el superávit obtenido al menos en parte a gastos de capital

firmemente que se debería flexibilizar su aplicación yendo incluso más allá de las citadas inversiones financieramente sostenibles cuya materialización en el ejercicio dos mil veinte

estableciendo por ejemplo unos valores más elevados de la tasa de referencia por su parte la deuda pública en dos mil veinte

y en nuestro caso a finales de año estaremos cercanos al doce por ciento

cerca de trescientos ochenta y cuatro millónes menos que en dos mil diecinueve

osasun hezkuntza eta gizarte politiketara asimismo el ejecutivo vasco sigue apostando por la inversión pública analizando la evolución del conjunto de las inversiones transferencias de capital y aumento de activos financieros se observa un incremento de la inversión hasta del diez coma dos por ciento

lo que supone ciento uno coma cinco millónes más que el pasado año

hasta alcanzar el pcti cuatrocientos ochenta y seis coma seis millónes veinticinco millónes más

pasando a analizar el presupuesto por departamentos sectores de actividad y políticas públicas muy brevemente hay que decir que el departamento de salud vuelve a ser

mayor presupuesto tres mil novecientos cuarenta y dos millónes de los cuales

se destinan a osakidetza y quinientos cuarenta y cuatro millónes a farmacia

y los conciertos sanitarios en doscientos treinta y cinco coma cinco

triplicando la cifra de años anteriores para la construcción de nuevos centros de salud y reformar las actuales instalaciones educación por su parte cuenta con dos mil novecientos diecinueve coma dos millónes de euros

y una parte considerable de estos recursos van a la universidad del país vasco trescientos veintitrés coma cinco millónes de euros el departamento de empleo y políticas públicas el tercero en cuantía presupuestada con mil ochenta millónes

una dotación sin embargo ampliable para la cobertura de derechos subjetivos en este sentido el proyecto contempla la actualización de las cuantías de la renta de garantía de ingresos sin prejuicio de la mejora acordada para su inclusión

por su parte el esfuerzo en políticas de empleo será aún más sustancial al incrementarse los créditos de pago y compromiso en torno a treinta millónes de euros

además el departamento destinará ochenta y uno coma tres millónes a la política familiar y comunitaria y veintisiete coma cinco a las ayudas de emergencia social por su parte el departamento de desarrollo económico e infraestructuras cuarto

cercano a los noventa y siete millónes de euros de este incremento setenta y cinco millónes se aportarán al fondo finkatuz por lo que el instituto vasco de finanzas pasará a disponer

en empresas vascas y potenciar su arraigo como ustedes saben en estos dos últimos ejercicios el gobierno vasco ya ha procedido a la adquisición de pequeñas participaciones

los créditos de gestión de la y vasca y la variante sur ferroviaria en dos mil veinte

trece coma nueve millónes de euros los programas incluidos el plan de ciencia tecnología e innovación y las cuantías dirigidas al sector primario a través de diferentes sociedades públicas

de ciento cincuenta y cuatro coma uno millónes de euros seguridad gestionará seiscientos sesenta coma cinco millónes de euros con un incremento de doce coma dos millónes el setenta y cinco por ciento de esta actuación se destinará a gastos de personal el departamento de cultura y política lingüística crece hasta los doscientos setenta y seis coma tres millónes experimenta un aumento

a su vez medio ambiente planificación territorial y vivienda cuenta con doscientos treinta y seis millónes de euros con doce coma siete millónes más que el año diecinueve

ihobe visesa alokabide y además se implementan siete coma cinco millónes dos coma cinco millónes más que el año pasado

juvenil trabajo y justicia maneja doscientos veinticinco coma siete millónes de euros y la cuantía

y de osalan doce coma tres millónes de euros por su parte lehendakaritza contará con ciento veintiséis coma seis millónes de euros en dos mil veinte con incrementos en emakunde

se verá sensiblemente incrementada tras la materialización del acuerdo alcanzado también se incrementa el fondo de innovación y el presupuesto

hasta llegar a los cuarenta y nueve millónes de euros aurrekontu proiektuan ehuneko

ondorioz batez ere turismo comercio y consumo por su parte incrementa su presupuesto hasta los cuarenta y dos coma seis millónes de euros uno coma cuatro más que el año anterior por lo que hace al texto articulado el proyecto de ley de presupuestos generales para el dos mil veinte

trece disposiciones adicionales seis disposiciones finales y cuatro anexos que lo complementan el título uno como novedad por primera vez se incluyen los presupuestos del consorcio científico tecnológico vasco basque research and technology alliance así mismo no se incorporan los presupuestos de la fundación hobetuz

fue autorizada al consejo de gobierno el pasado mes de julio el título segundo contempla en relación al contenido de los presupuestos diferentes disposiciones relacionadas

con respecto a las retribuciones vigentes en el ejercicio dos mil diecinueve

y al igual que en el año anterior también se prevé la posibilidad de realizar aportaciones a sistemas de previsión social con el límite máximo del cero coma cinco por ciento de dotaciones para

en relación a los ingresos además de las aportaciones de las diputaciones forales se prevé un incremento del uno por ciento en las tasas de la hacienda general

que de una manera no estructurada establecen determinadas especialidades respecto al régimen general de ejecución presupuestaria entre dichas disposiciones sin prejuicio de las posibles modificaciones que puedan llevarse a cabo en la posterior tramitación en comisión se incluye el incremento de la cuantía de la renta de garantía de ingresos

para la prestación complementaria de vivienda y para la prestación económica de vivienda

sozietateetan erabakiak hartzeko jarraibideak ere el proyecto de ley se completa con seis disposiciones finales que modifican las disposiciones legales tales como el texto refundido

en relación con el canon del agua o la ley de retribuciones de altos cargos autorizan al gobierno para el desarrollo y ejecución de la ley y establecen su entrada en vigor

del canon del agua busca simplificar y facilitar la gestión de la recaudación y el cumplimiento de las obligaciones tributarias al tiempo que se amplía la base imponible a otros usos consultivos del agua los principios de equidad y gestión eficaz sin embargo sus efectos se trasladan al uno de enero del dos mil veintiuno con el propósito de facilitar la adaptación

por último ante la eventualidad que durante el ejercicio dos mil veinte

pudiera dictarse disposiciones con carácter básico en relación con los gastos de personal al servicio del sector público

para proceder a la adecuación de dichas normas al régimen y condiciones retributivas del personal al servicio del sector público de la comunidad autónoma de euskadi el articulado de la ley se completa con cuatro anexos cada uno de los cuales se refiere respectivamente a los créditos de compromiso que se crean el año dos mil veinte

y la composición de los módulos económicos para los conciertos educativos estas son en definitiva las principales magnitudes y características del proyecto de la ley

dos mil veinte un proyecto que conscientes de la posición del gobierno

y sabedores de la minoría parlamentaria para la aprobación presupuestaria hemos tratado de consensuar y acordar con los grupos de la oposición con el fin de procurar su aprobación en esta cámara

se ha logrado un acuerdo y euskadi tendrá presupuestos vigentes

para ello se mantuvieron contactos con los tres grupos de la oposición ya a finales del mes de junio

cuando se aprobaron las directrices presupuestarias para dar cuenta de las mismas algo relativamente insólito pero que se entendió necesario al estar

y por muy actualizada que esta hubiera quedado tras la aprobación de las tres leyes complementarias

de febrero así bastante antes de la aprobación del proyecto por parte del gobierno brindamos la oportunidad de poder escuchar las propuestas de los grupos parlamentarios de cara a fijar

entendían importantes para que el proyecto llegara a buen puerto les dimos cuenta del marco presupuestario

incluyendo los requerimientos que de cara a realizar la asignación de recursos suponía el incremento salarial

de conformidad a los parámetros de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera de las cuentas vascas y el resto de las prioridades derivadas de las políticas públicas como innovación

aurrekontuen negoziaketan si el día once de noviembre fecha de presentación en comisión del proyecto aprobado por el gobierno apelaba a la responsabilidad de los partidos de la oposición para llegar a un acuerdo lo más amplio posible

positivos para la ciudadanía también dije que buscaríamos un acuerdo con quien realmente tuviera voluntad de negociar y quisiera acordar en esos

y de políticas sectoriales razonables sin entrar en aventuras económicas insostenibles que hipotecasen el bienestar de la ciudadanía o la igualdad social necesaria para la cohesión general y a ello nos hemos dedicado las semanas que han antecedido a esta sesión plenaria

un presupuesto con variaciones era posible viable y necesario

ni imposible de cumplir por irreal y por inviable económicamente

que para comienzos de noviembre ya había planteado públicamente unas iniciativas inasumibles con bajadas impositivas de impuestos y modificaciones de los coeficientes de aportación al gobierno vasco

en los grupos de elkarrekin podemos y eh bildu que habían mostrado su voluntad negociadora en el momento de presentar el presupuesto ante la comisión

se incorporaba a la negociación el mismo día siguiente al final de la presentación de los presupuestos en comisión el grupo de eh bildu por el contrario

cara al público más que al gobierno casi quince días después de dicha presentación a aquella reunión eh bildu acudió

y el gobierno se mostró abierto a recibirla para poder analizarla

si ya desde las formas contrastar esta manera de actuar con una verdadera voluntad negociadora que debe estar presidida por la discreción suponen un reto la lectura del contenido de la plataforma negociadora basada entre otras

a las que hicieron fracasar la negociación presupuestaria del pasado año no situaba el fondo de las posibilidades de acercamiento negociador con este grupo en parámetros de viabilidad

que hizo el mismo día veintiséis por la propuesta remitida

con que salió la coalición a manifestar que sabe leer entre líneas

amén de sugerir que había ya un acuerdo con elkarrekin podemos indicaba

en buscar justificar una negativa negociadora por parte del gobierno que ser positiva y

su propuesta presupuestaria ocultando de nuevo como el año pasado

de desgaste al gobierno y a los partidos en él representados de pedir cuestiones

gertatu zena errepikatzen du eszenatoki horrek por el contrario desde el primer momento incluso diría yo desde febrero de este mismo año

de sus postulados ideológicos pero consciente de la necesidad de cambiar a la praxis político institucional elkarrekin podemos ha adoptado una actitud negociadora que conjuga utilidad social con pequeños pero significativos pasos

que los que se buscan denostar que los que buscan denostar el acuerdo un día sí y otro día también quieren hacernos creer dijimos que buscaríamos un acuerdo con quien realmente

y así lo hemos hecho con elkarrekin podemos único grupo que ha querido entrar en una negociación que ha dado entiendo un fruto extraordinariamente positivo

ha resultado complejo porque ambas partes hemos tenido que admitir

de la complejidad social y económica y el marco de funcionamiento institucional y normativo por ello lo primero que debo hacer es agradecer agradecer de verdad la actitud

es evidente que no es el presupuesto del elkarrekin podemos pero tampoco es el presentado por el gobierno

muy significativos en el pormenor de gastos que escoran políticas públicas muy importantes hacia terrenos en los que se visibiliza una incidencia crucial de elkarrekin podemos y el conjunto de la sociedad vasca mover el marco de las cuentas públicas de dos mil veinte ochenta y ocho millónes de euros de un total de trescientos

sino una gran incidencia todo ello sin contar con la asignación

plurianual el contenido de la oferta gubernamental así como

el esfuerzo de mejora presupuestaria en tres materias de importancia capital en los días en que vivimos las políticas feministas y la lucha contra la violencia machista

dira datorren urteko aurrekontuan no voy a reproducir aquí todo el contenido del acuerdo por haberse hecho público

los avances que en mi opinión han puesto en cierta transformación

y lucha contra la violencia machista se incluyen acciones dirigidas a mujeres víctimas de la violencia sexual y violencia de género planes de formación en igualdad para el personal público

víctimas y en mujeres mayores que en muchas ocasiones tienen más dificultades para llegar a los cauces habituales o desconocen incluso que están siendo víctimas

afectivo sexual en educación infantil primaria secundaria para prevenir los abusos sexuales lo que a ambas partes nos parece clave para avanzar hacia una igualdad real

de violencia machista en el marco de las medidas contra el cambio climático se han dado importantes pasos también en los ámbitos de la transición energética con ayudas y subvenciones que ayuden a dicha transición destacando la constitución de una herramienta financiera

energética para apoyar a entidades locales con el fin de facilitar las inversiones a realizar en su aplicación lo que va a implicar una modificación del articulado

la ciudanía recibirá formación para poder analizar las tarifas de la luz y prestará una atención especial a las zonas de actuación prioritaria

novedoso es a su vez el acuerdo que hemos alcanzado para una línea de ayudas el plan renove

mediante este acuerdo se adoptarán medidas para contar con más información en distintos sectores de la afección que supone adaptarse al cambio climático con informes elaborados por los pueblos clústeres inversiones

trascendente en este campo la dotación económica de un nuevo fondo de capital riesgo o la ampliación

pero afectadas por operaciones de desinversión o por salidas abruptas de capital de empresas familiares algunos de los puntos clave de este acuerdo en protección social son el incremento del cuatro por ciento en la renta de garantía de ingresos

para unidades de convivencia monoparentales o el aseguramiento de una transición ordenada y garantista entre la prestación complementaria de vivienda

a la vivienda también se contemplan varias iniciativas pioneras de cohousing en colaboración con los ayuntamientos dirigidas a jóvenes y a personas mayores aspectos que pese a lo que se diga suponen avances palpables en materia social y de protección en euskadi

que ha requerido afinar más en la negociación pero que se ha visto que si de verdad se quiere

ha sido la educación de cero a tres años en el que se ha pactado la apertura de nuevos centros del consorcio haurreskolak así como una reducción del diez por ciento en las tarifas actuales tanto el año dos mil veinte dos mil veintiuno y una revisión de los tramos de rentas con el fin de favorecer a las familias con menores ingresos y familias monoparentales además se va a incrementar en diez millónes de euros el plan de infraestructuras educativas de dos mil diecinueve dos mil veintitrés priorizando las nuevas inversiones a realizar

así como en función del índice de necesidades educativas se actuará también

con ayuntamientos tanto el gobierno vasco como elkarrekin podemos hemos coincidido en la importancia de seguir trabajando en el fomento del empleo y en el desarrollo económico de euskadi y así se prevén múltiples acciones en formación apoyo a las empresas apoyo a la creación de empleo medidas de apoyo al comercio local al empleo juvenil

estas medidas irán destinadas prioritariamente a las personas desempleadas de larga duración mujeres en situación de vulnerabilidad y jóvenes

el área de salud ha sido uno de los ámbitos que también ha tenido importancia en la negociación hemos consensuado la creación de unidades especializadas

con problemas de salud mental y se ha dado un paso importante en la atención primaria con el compromiso de proceder en el periodo dos mil veinte dos mil veintidós a la creación de noventa y dos

al margen de las cuarenta y seis plazas contempladas en la estrategia de atención primaria en las categorías de enfermería farmacéuticos de atención primaria fisioterapeutas y auxiliares administrativos además se ha establecido una dotación presupuestaria importante destinada a la prevención y tratamiento

y otras adicciones sin sustancia en euskadi como ven sin duda que euskadi

de todos y de todas y quiero poner en valor este acuerdo que considero de capital importancia

sino también porque de alguna manera es un pequeño hito

política presupuestaria con unas cuentas que este país necesita y no había aprobado con el consenso de elkarrekin podemos como tal formación nunca

realizado a elkarrekin podemos para alcanzar este acuerdo soy consciente de que

pelear por las políticas públicas prioritarias sabedores de las limitaciones existentes mirar por el bien de la ciudadanía vasca y abrir nuevas relaciones políticas desde una diferencia ideológica capaz de lograr consensos agradezco de forma especial la confianza en la que

entre ambos equipos euskadi va a contar con un presupuesto aprobado en dos mil veinte eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari señor consejero negociamos con quien quería

se negaron a negociar la prórroga de los presupuestos con el partido popular usted tres veces nos reunimos

ahora hoy nos ha dicho que podemos ya era más flexible en aquella época

el pacto de este presupuesto que está hecho en madrid evidentemente está desde el mes de junio y que sus directrices

hablando de igualdad y cambio climático en este presupuesto

porque todos sabemos que de los cuarenta y cinco millónes de euros que suponen las partidas de este pacto eso es una filfa

por lo tanto no nos venga usted aquí a decir que es que

pero cuando hemos entrado sabe qué decían ahí estefanía incumple los acuerdos eso era cuando entrábamos estefanía incumple los acuerdos bueno todo el gobierno vasco incumple los acuerdos

los que acuerdan con sindicatos o los que acuerdan con otros grupos porque le voy a recordar que cuando nosotros dijimos en junio

y qué nos dijeron que no que no por qué porque ya estaban en lo que estaban a ver si yo entiendo perfectamente que al partido nacionalista vasco le interese un gobierno de podemos en madrid y a cambio de esos votos pues aquí asistimos a lo que asistimos pero no nos venda el muñeco vistiéndolo

si no se han sentado en ningún momento a hablar de la reforma del irpf de la que hablamos pero nadie

mire nosotros pactamos dos ejercicios los presupuestos con ustedes los incumplieron los dos

alguien sabe dónde están por dónde discurren se ha hecho algo

para ayudar a las familias con hijos se ejecutaron o se desvió el dinero a otras partidas se desvió señor azpiazu

pero no le voy a hablar ya del diecisiete dieciocho la prórroga que usted aprobó

que son de obligado cumplimiento también las ha incumplido sí sí señor sí tanto que hablan de igualdad y todas estas cosas usted ha incumplido

o sí sí de mujeres no las han cumplido incumplido pero luego hablamos mucho de igualdad le recuerdo en educación

no le gusta al señor lehendakari lo que décimos le recuerdo en educación lo que se iba a hacer la reforma de la educación la ley de educación que iba a venir

cero tres oiga y en la concertada si no existe si no existe

en el diecisiete y en el dieciocho no existe de cero a tres años no existe y el inglés

por lo tanto en fin qué quiere que le diga no es un gobierno muy creíble no para nosotros que no

que son sus funcionarios que le dicen que incumple sus acuerdos

que viene hace ya más de año y medio el partido nacionalista vasco decidió cambiar de socios cambiar de política

llegaron a un acuerdo con bildu para liquidar el estatuto y la constitución española en el país vasco ahora no sé si se están remodelando o no

eso durante este año y medio qué es inestabilidad inestabilidad el crecimiento

el empleo ya no va como iba y los empleos que se crean son ínfimos

de hecho el cincuenta por ciento de los empleos señor consejero en estos momentos en el país vasco los acaparan los extranjeros

y yo sabemos son los más preparados los que más títulos tienen a todos los niveles y por lo tanto son los que mejores sueldos tienen y los que más cotizan ese es el empleo que se está creando en este año por este gobierno con las medidas de este gobierno

el gobierno vasco porque un gobierno vasco usted nos ha reconocido que ha tenido superávit estos tres años y fíjese que teniendo superávit

cada año más de quinientos y este año va a cerrar con más de quinientos

a no va a hacer magia bueno pues a lo mejor tiene todavía

y pese a tener superávit de más de quinientos millónes pese a batir los récord de recaudación del irpf

es que ni siquiera ha cumplido las partidas que tenían no le costaba tanto no era tanto dinero

y qué presupuesto nos trae un presupuesto que como usted dice es inferior en diez millónes al del año pasado sí sí pero es que

al ejecutado del dieciocho también es inferior al ejecutado del dieciocho y qué hace este presupuesto

sí incrementa la inversión es el menos inversor el menos inversor señor consejero de toda la legislatura y eso que hace trampa y mete el capítulo ocho para ver si sumando el capítulo ocho al capítulo seis y siete nos da para decir

pues porque este cambio de socios produjo también un cambio de gobierno en madrid y ese cambio de gobierno en madrid implicó que a la y griega se le daba una patada mínimo de dos años para allá

y se dejaba de invertir porque eso por lo visto la llegada del ave al país vasco no está en la agenda vasca antes estaba pero ahora ya no está ya no se le oye hablar a este gobierno vasco de la llegada del ave

no solo no lo reclaman sino que en los presupuestos se cae la ejecución del ave y por eso la inversión que por cierto es la inversión más grande

se cae porque no es una prioridad de este gobierno pero esa inversión sin embargo sí es de las que crea empleo a ver y no es un empleo de ínfima calidad

todos los ingresos de más que tiene este año usted los dedica a incrementar el gasto corriente el gasto corriente

en qué en qué medios de comunicación social en euskera al margen de etb que a etb usted ya les sube quince millónes de euros y con el pacto que tienen

empeora todas y cada una de las partidas del presupuesto que nos han traído todavía como quince millónes de euros más son pocos

vamos a gastarnos en e i te be más de ciento sesenta millónes de euros

y nos ahorramos ciento veinte millónes al año porque para hacer una televisión sectaria que no la ve casi nadie pues digamos que esos ciento veinte millónes de euros los podíamos utilizar en más cosas es un presupuesto

y además lo hacen a propósito y lo hacen para no rebajar los impuestos a los ciudadanos lo hace

a decirnos que es que hay propuestas que son inviables son inviables con su presupuesto

usted dispara el gasto corriente en todos los aspectos sí sí señor consejero hombre a usted le molesta que le llamemos podemita de vez en cuando verdad pero es que usted

en qué se diferencia sus políticas y lo que usted hace de cualquier dirigente griego

que al griego desde bruselas le dicen que tiene que bajar el cuarenta por ciento las pensiones

de que aquí ha gobernado el partido popular y eso no ocurrió pero todo lo demás todo lo demás qué está haciendo usted

en el dos mil trece porque había que pagar el gasto corriente del gobierno vasco se han batido todos los récords

incluso el número de entes sociedades y demás iba a decir chiringuitos pero alguno no lo es verdad

innecesarios innecesarios

por lo menos una secretaria por lo menos un local coche sueldos eso es lo que está haciendo este gobierno

nos están planteando aquí y por qué penaliza el sector privado porque

son los que viven del gobierno vasco a esos se les sube el sueldo sustancialmente

las subidas que plantea este gobierno a todos los niveles hombre el más escandaloso es el de la rgi ya sin el acuerdo

no es que lo empeore o sea nos da el modelo de país al que aspira el partido nacionalista vasco y es una sociedad

y de tramposos porque ustedes con esas políticas y se lo dijimos hace ya muchos años parecía que habían aprendido algo dejaron la indexación

con el salario mínimo la quitaron y ahora

pues están consiguiendo que no sea rentable trabajar legalmente es más rentable

y trabajar en negro por el otro no cotizas no pagas impuestos y al final pues te llevas dos mil euros por hacer lo mismo y esta

empeorados con los de podemos es la política que porque efectivamente señor consejero un presupuesto es política qué política es usted incentiva

subir los impuestos tiene usted en este presupuesto llevamos un año hablando de desaceleración económica tiene usted alguna medida en este presupuesto

para fomentar el empleo alguna novedad no llevamos un año este año alguna novedad respecto al presupuesto del año pasado y que nos trajo usted estábamos en crecimiento crecíamos casi un tres por ciento ahora estamos bajando el crecimiento baja la creación de empleo

es malo es que no le he oído ninguna también se lo pregunté en la comisión el otro día

el señor consejero es capaz de decirme alguna medida novedosa para fomentar el empleo para fomentar el crecimiento económico el año dos mil veinte

bueno con el impuesto de sociedades pasaba lo mismo pero donde sí que tienen ustedes capacidad fiscal qué ha hecho subirlo

en esta ley de presupuestos que van a aprobar aquellos señores de allí por cierto

sí señor consejero sí que yo estaba en la comisión cuando el señor consejero de medio ambiente le preguntamos oiga pero esto dice viene de hacienda y me parece bien porque vamos a recaudar más que es la función de este gobierno recaudar más de los ciudadanos qué ha hecho usted

que grava la toma del agua y paga el consumidor lo que se pierda en el trayecto que es responsabilidad de quién

por lo tanto es fantástico cuanto más despilfarro haya más recaudo esto es lo que han hecho ustedes han sustituido el que más consume paga más

voy a cobrar más cuanto más se despilfarre y así hay que recaudar más más del cien por ciento más del ciento cincuenta por ciento va a recaudar más sí sí

y muy ecologista no parece por eso le he dicho que aquí hay mucha filfa ecológica y mucha filfa

que todos sabemos que continúa con los recortes

funcionarios de hecho el señor consejero poco más o menos nos vino a decir que estábamos poniendo en riesgo la economía vasca

profesores y profesoras por cierto sector feminizado

si se cumplían las obligaciones que tenía el gobierno vasco con ellos eso poco más o menos que quebraba el gobierno

que por lo visto para esas cosas no tiene dinero pero para crear nuevos derechos a los altos cargos

o a los miembros del gobierno sí tiene dinero porque claro para incumplir los acuerdos del gobierno vasco con los funcionarios no hay dinero pero para que los altos cargos miembros del gobierno y personal de confianza

sí sí esta es su disposición adicional en el presupuesto

para algunos sí que hay sector público siguen sin simplificar nada se lo he dicho antes

se lo décimos todos los años todos los años pero bueno luego hablaré de la nueva sociedad que pretenden ustedes crear

probablemente del presupuesto que usted nos ha traído sea lo que se refiere a la educación concertada después de la huelga que hemos tenido hasta hace escasamente un mes que usted nos traiga un presupuesto en el que los sueldos de los profesores de la concertada

sí sí señor consejero sí en el cero coma ocho y sigue congelado desde hace once años ya el módulo

es que en el acuerdo que han firmado ustedes cuando se refieren a la educación concertada dicen

pues vaya una forma de garantizarla no hay dinero para todos

salvo para la concertada supongo que dentro de unos meses tendremos otra huelga pero será culpa de los centros no de este gobierno

tienen un párrafo referido en el acuerdo sobre la concertada y dicen se garantiza la libertad de los padres de elegir el centro tiene que ser gratuita

señor consejero y la conclusión a la que llegan es que tiene que haber más inspecciones en la concertada inspecciones será para ver si el gobierno cumple alguna vez con sus obligaciones de verdad

de elección de centro cosa que no hace porque le cuesta dinero pero es mejor gastarlo en otras cosas en embajadas en etb en el sur de francia en los que viven del euskera

pero para la concertada para los derechos fundamentales de los ciudadanos de los vascos para eso no hay para eso no tenemos dinero

que dice que se crea no es verdad no crea usted nada no se crea ningún fondo

crea un apunte contable en el instituto vasco de finanzas

habrá que fijar los criterios de inversión y desinversión que es lo que viene por escrito por cierto en la memoria con lo cual no es ninguna novedad pero no nos diga que han creado el fondo no han creado ningún fondo ha creado una cuenta una cuenta

una cuenta y yo quiero recordarle a la señora consejera del ramo que cuando nos planteó la creación de este fondo al principio de la legislatura que nosotros la apoyamos

era la creación de un fondo público privado para invertir en empresas solventes viables y no en bolsa bien y ustedes qué nos traen en esta ley nos traen un apunte contable la creación de una sociedad pública cien por ciento para gestionar ese fondo

al final para comprar acciones oiga pero sí ya han comprado acciones que según ustedes están en el y no hacía falta ninguna sociedad han comprado de caf han comprado otras

dónde está el fondo público privado qué ha sido de él ah claro es que para que los privados entren había que hacer reformas fiscales

que no se han hecho ni se van a hacer y al final pues alguien en vez del finkatuz le llama trinkatuz no porque dice bueno vamos a crear aquí un fondo

en ya veremos qué empresas las que nos interese al pnv para garantizar qué pues para garantizar determinados

nosotros apoyamos lo que apoyamos desde el principio hace tres años que era la creación del fondo público privado

ni nada parecido y menos para crear otra sociedad pero ya lo que es ya paradójico es que el acuerdo con podemos

podemos hace una enmienda y dice bua esto es poco

la sociedad pública que se va a crear con el fondo este pero qué

como usted comprenderá nosotros en fin a esos juegos no vamos a entrar nuestra alternativa

nosotros sí planteamos incrementar la inversión señor consejero

en más de sesenta y en más de setenta millónes de euros planteamos incrementar la inversión y apoyar a los emprendedores

y los parados de larga duración y en las ayudas a la familia como son ustedes unos chapuceros hemos considerado ya que lo que hace falta es mire vamos a hacerla universal

para que todas las mujeres que tengan un hijo tengan derecho a esa ayuda todas sin excepción y así la señora consejera no hará trampa

y estas no todas y fíjese no es tanto dinero

ahora como no es de las cosas que a usted le gustan pues a lo mejor le parece que eso quebraría el presupuesto del gobierno vasco no se preocupe no lo quiebra

esa ayuda y por supuesto que desde los dos años la educación infantil sea gratuita para todo el mundo señor consejero no solo para los de la pública para todo el mundo también para los de la concertada

y en definitiva señor consejero porque se me está acabando el tiempo nos han traído un presupuesto que no ayuda para nada a crear empleo de calidad sino todo lo contrario

falta de inversiones públicas va a crecer la rgi en un año

van a favorecer la economía sumergida es una opción porque es una decisión política desde luego nosotros estamos en contra

aquella que hablamos y firmamos en su día que tenía que favorecer a las rentas medias y bajas

no la van a hacer se han negado a hacerla porque sabe que son los que más pagan

y que toda esta broma suya se mantiene con esa recaudación

con las rentas medias y bajas no con las altas esas que usted dice no con el impuesto de sucesiones ni con el de patrimonio no esos consigue ahuyentarlos a todos y que recaudemos menos con los que usted recauda a esos a los que había que bajarles este año

como tocó en españa hace dos años ya aquí también tocaba pero ustedes han decidido que no toca y cuando

a los empleados está muy bien pero es para que les suba el tramo y cobrar más irpf

mejores sueldos la gente que está en la calle y este es un presupuesto pues que evidentemente

por el pacto que tienen ustedes con podemos como se lo he dicho responde al gobierno de podemos en madrid más impuestos para todos y más gasto corriente bueno igual que el suyo tampoco es ninguna novedad lo que va a ocurrir en madrid

más gasto corriente y más subida de impuestos esto es el pnv ahora y más gasto social si usted quiere le llamamos gasto social a todo todo es gasto social

ahora para los vascos la política del partido nacionalista vasco en este último año y medio nos está yendo bastante mal nos está yendo bastante mal usted está viendo como muchas comunidades autónomas nos están alcanzando

incluso de crecimiento de sueldos en la calle digo los de la calle no los del gobierno digo los de la calle

nos están pasando vemos como en educación pues vamos

eso sí somos los que más gastamos pero con mucha diferencia señor consejero

líos de las oposiciones fraudulentas y todo eso la percepción de la gente en la calle es que ya no era tan buena

claro cuando los centros de salud hay alguno que lleva unos cinco años previsto en los presupuestos y no se ejecuta nunca nunca

yo espero señora consejera que si algún día la inaugura me invite porque me gustaría verla con estos ojos que se hace algún día esa lonja señores del gobierno del partido nacionalista vasco

a favor de que este presupuesto lo devuelvan al cajón tenían la posibilidad de hacer otra cosa buena

menores ingresos fiscales en principio señor consejero para el año que viene porque usted nos ha planteado un presupuesto con menores ingresos que el del año pasado pero no a costa

porque ahorra ha decidido ahorrar para cuándo señor consejero cuándo hay que tomar medidas cuando la economía no va bien cuando está usted el suelo o antes para que no llegue hasta el suelo

usted tenía la posibilidad de hacer un presupuesto muy inversor

y eso también es una decisión política de este presupuesto y de este gobierno y por lo tanto como les decía pues evidentemente

proyecto de presupuestos del gobierno vasco para el dos mil veinte que no solo es malo sino que va a salir todavía mucho peor de lo que entró a esta cámara

sí gracias presidenta egun on denoi el grupo socialista viene a este debate a votar sí a un proyecto presupuestario

para que desde la acción de gobierno se atendieran las urgencias inmediatas de euskadi y se pusieran los pilares para afrontar

un marco de estabilidad en el que la presencia de los socialistas vascos en el gobierno ha conseguido que queden al margen de las cuentas públicas al margen de los ingresos y de los gastos

y por tanto apoyamos unos presupuestos para euskadi en dos mil veinte en los que nadie va a encontrar un solo euro destinado a la cuestión principal

política económica o financiera de euskadi se pueden tener otras ideas de cómo hacer las cosas se pueden realizar aportaciones y se pueden buscar incluso

están planteados con rigor en el gasto responden a un programa de gobierno y estos presupuestos son responsables

porque un gobierno en el que estemos los socialistas va a ser siempre responsable con la ciudadanía alguien dijo en esta cámara hace un año que el partido popular no había pasado el duelo y hoy siguen en las mismas el partido popular todavía chapotea

y lo lamentable es que pretendan que nos salpique ese chapoteo a los socialistas y a la ciudadanía vasca el partido popular no tuvo pudor en pactar con el partido nacionalista vasco unas cuentas en españa el mismo día que en euskadi el partido popular acordaba con euskal herria bildu

que hoy reniega el partido popular por eso no están ustedes en condiciones de dar lecciones con su propuesta de ciento cincuenta y ocho millónes de euros en administración general

de tres millónes y medio de euros en organismos autónomos y de veintiuno millónes euros en entes y sociedades públicas no pueden señoras y señores del pp disfrazar de enmienda de totalidad lo que no es más que su frustración

y por no haber podido recuperarlo en las dos elecciones que hemos vivido después estaba en su mano solo en la mano del partido popular vasco o partido popular en el país vasco como dice su presidente nacional el haber adoptado una decisión valiente

para eso hicieron una conferencia hace un par de meses o al menos es lo que algunos creímos pero parece ser que solamente sirvió para sellar paces internas y obviar la responsabilidad del partido popular con los vascos y las vascas y créanme que lo lamento porque los socialistas hemos dicho siempre que estábamos abiertos a pactar las cuentas y las políticas sectoriales con todos

en los plenos ordinarios de esta cámara y hemos dado sobradas muestras de qué era lo prioritario para los socialistas vascos en una negociación presupuestaria

no hemos partido nunca de vetos gobernara quien gobernara en españa ustedes no pero allá el pp con su estrategia y con su actitud y si lamento

es por el daño que están haciendo cuando siguen proclamando que está vigente el proyecto político de eta cuando callan al escuchar a alguien de su partido decir que hoy es más difícil

que cuando nos mataban a ustedes y a nosotros hoy es mucho más fácil hacer política ustedes lo saben hoy es más fácil hablar con unos y con otros pactar entre diferentes es algo que ustedes practican además a menudo en esta cámara y es más fácil

es una gran victoria de la sociedad y para la sociedad les invito de verdad a que se lo crean de una vez

y a nosotros y es más fácil hacer política es más fácil hablar y pactar y así cuando ustedes han querido han participado de los presupuestos en euskadi y cuando toman la decisión de no participar son otros grupos parlamentarios

y los que intentan pactar hace un año se les vio felices de poder compartir con euskal herria bildu y con elkarrekin podemos el rechazo a los presupuestos de euskadi para dos mil diecinueve luego tres leyes de medidas presupuestarias urgentes

con la renta de garantía de ingresos con relación a las retribuciones y en materia educativa en febrero de este año han permitido al gobierno vasco no frenar

de los funcionarios públicos hoy no sé no sé de verdad si están igual de felices por compartir el rechazo presupuestario con euskal herria bildu y con ezker anitza

y lo que destila su enmienda a la totalidad es una aversión a lo público y a la protección social hablan de los funcionarios como si no fueran los maestros y las andereños que enseñan en nuestras escuelas el personal médico y de enfermería que nos atienden

y hablan de las personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos como sujetos sospechosos de querer vivir sin trabajar olvidando que la cuarta parte

y que la mayoría del resto de personas perceptoras entran y salen de la red de protección

oportunidades porque señor damborenea y señoras y señores del partido popular si cobrar la renta de garantía de ingresos es un chollo por qué hoy hay

por qué el grupo de afiliados a la seguridad social que más crece en euskadi es el de las personas que llegan de otros lugares por qué no dejan de señalar con el dedo

y a los que vienen de fuera cuando se han evidenciado en multitud de ocasiones las mentiras que les dejó delegado el señor maroto antes de empadronarse en sotosalbos hoy el mayor porcentaje de personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos son personas autóctonas

mujeres que aspiran a no ver cronificada su situación a salir del tema de la renta de garantía de ingresos y a poder ganarse la vida dignamente trabajando en un empleo de calidad ustedes sitúan su gran prioridad educativa en la enseñanza concertada

en el sistema educativo vasco en general y miren la enseñanza concertada está cumpliendo un papel esencial en un sistema que tiene como garantía la educación pública de calidad bien sea prestada directamente o a través de unos centros concertados

mediante la negociación colectiva ese instrumento tan valioso que fue enterrado con la reforma laboral y que se debe recuperar porque se centra en conseguir y consolidar derechos laborales y derechos salariales se han ganado hace nada y es difícil de entender que el partido popular pretenda ahora introducir elementos de distorsión

cuando no hay ninguna razón para ello y vuelven en su enmienda de totalidad al asunto de la fiscalidad con esa frase que incluso ponen en negrita sobre el compromiso de revisión del acuerdo firmado hace dos años en dos mil diecisiete y saben que no es verdad saben que esa revisión la íbamos a hacer tras una evaluación de resultados

porque los efectos fiscales hay que verlos en perspectiva y porque como le sonará el año que viene habrá elecciones autonómicas en euskadi y un futuro gobierno deberá acordar con las diputaciones forales recientemente renovadas

si fueran necesarios en dos mil veinte se abordarán muchos más asuntos sobre la fiscalidad que los que dice el partido popular en un raca raca del que no sabe salir sobre bajadas de tipos de interés perdón de tipos fiscales y sabiendo todo eso que lo saben es un despropósito que el partido popular

justo unos meses después de haberlo firmado y sellado cuando en álava acordó con elkarrekin podemos y euskal herria bildu romper la armonización comprometida

con los acuerdos suscritos y el que firmamos sobre fiscalidad hace dos años aquel tan demonizado por algunos y ese del que parece ahora

ha demostrado el acierto y el rigor de su implantación y es sobre esa base desde la que se han elaborado estos presupuestos que van a aprobarse

porque en dos mil veinte crecerán los recursos disponibles para atender la sanidad la educación la renta de garantía de ingresos la vivienda y en definitiva los servicios públicos básicos

que la reforma fiscal de dos mil diecisiete cuyo recorrido comenzó en el año dos mil trece se hizo pensando en el futuro y no en la siguiente campaña electoral y eso vistos los resultados hoy es una buena noticia

se ajustan a la realidad que cuando se piensa en fiscalidad los socialistas vascos hablamos de cuántos recursos necesitamos para impulsando el crecimiento económico

sistema fiscal es un sistema progresivo en el que se contribuye de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente y se ha confirmado el acierto estratégico

hace dos años y se ha cumplido lo que dijimos en este parlamento que iba a ocurrir esto es lo que se llama actuar con rigor en la gestión de los recursos de todas

y si entramos a analizar cada impuesto lo primero que detectamos es un importante incremento en la recaudación del irpf que responde no como dice el señor damborenea a un incremento de la presión fiscal sobre los trabajadores sino que se debe a un incremento en el número de trabajadores y esto también

y si analizamos el impuesto de sociedades vemos que se cumple también la previsión que hicimos aquí en tribuna con la última reforma fiscal

sobre tipos nominales que es lo que entretiene normalmente a quienes no gobiernan sino que la clave del debate debía y debe centrarse en los tipos efectivos tampoco podemos obviar la importancia de las medidas adoptadas en la lucha contra el fraude fiscal y la elusión fiscal cuando el año que viene lo que hacer un balance del comportamiento de cada impuesto que es lo que pactamos

aquí seguiremos estando sin elecciones sin reclamos fáciles y sin compartimentar impuestos para que cada cual intente rascar en un caladero de votos determinado

que estos presupuestos se devuelvan al gobierno para su relaboración porque estos presupuestos consolidan las políticas públicas que hemos emprendido esta legislatura

y la generación de empleo de calidad estos presupuestos cuentan además con la particularidad de la introducción de la perspectiva de género y el refuerzo medioambiental contemplado en el acuerdo de gobernabilidad y consecuencia lógica de la declaración de emergencia climática

en un asunto transversal del gobierno por tanto es un proyecto que refuerza el compromiso público firmado hace tres años entre los socialistas y los nacionalistas vascos que se ha trasladado además al desarrollo de la acción de gobierno y que ha servido para sostener para mantener y para reforzar los servicios públicos para generar

que asoman en el horizonte porque los riesgos están y los podremos afrontar y minimizar articulando políticas y medidas económicas y sociales

que están adaptados a las necesidades de la economía y de la ciudadanía vasca en dos mil veinte hemos intentado una negociación presupuestaria que compartiera estos pilares de nuevo una negociación abierta a todos los grupos parlamentarios

sin prejuicios ni vetos debatiendo solo sobre las propuestas hemos pretendido una negociación sin mirar a las urnas sin jugar a hacer campaña con las urgencias

estabilidad y certezas a la ciudadanía vasca y eso nos exige a los socialistas vascos rechazar las propuestas que como la enmienda a la totalidad del partido popular
basándose en datos que no son ciertos solo pretende sembrar incertidumbre y desazón muchas gracias eskerrik asko corcuera

pensaba agriarme en exceso en este primer turno

álvarez de toledo a soltar una serie

faltas a la verdad por no decir mentiras en un tono chulesco faltón que habrá que rebatir yo pensaba comenzar y lo voy a hacer felicitando al consejero de hacienda por el acuerdo conseguido a todo su

un cambio estratégico muy importante que será estoy seguro bueno para su partido pero seguro

para el país señor damborenea usted comienza con la mayor de las mentiras y es que le da la vuelta a la tortilla y dice que ha sido el gobierno el que no ha querido dialogar

vamos a ver comienzan diciendo yo recuerdo muy bien cuando bajó aquí carmelo barrio no está una lástima

que había habido negociación para la prórroga presupuestaria y que en esa negociación habían pactado el cumplir todas las subvenciones nominativas que

presupuesto prorrogado venían por tanto hubo pacto o no hubo pacto

nos miraba sorprendidos y usted le decía hable usted con el señor azpiazu y nosotros hicimos nuevo

era mentira dice usted que las subvenciones nominativas se le niega el pan

que no tiene qué comer eran subvenciones nominativas al club

al club de la petanca de no sé qué pueblo de álava

clientelares que daban vergüenza ajena señor damborenea vergüenza ajena sí claro nosotros ya conocíamos su fórmula la fórmula que promulgaba el pp que era adelgazar la administración pública y bajar los impuestos no y lo cierto es que en la lectura de las enmiendas nos hemos llevado un chasco porque

la inversión pública poco y lo que es bajar el gasto corriente menos ustedes tenían un contexto favorable para hacer un ejercicio y mandarle

nítido y es que el pp quiere adelgazar la administración y bajar los impuestos bueno pues esta segunda parte

no lo han hecho porque en fin su propuesta fiscal que últimamente no le hace tanta publicidad yo no sé si se avergüenza cada vez que le sacan los datos que se basaba en rebajar en irpf unos mil cuatrocientos mil quinientos millónes de euros en dos años

de financiación al gobierno vasco cambiando el coeficiente de distribución vertical de recursos ante diputaciones y gobierno y suprimir el impuesto de patrimonio que actualmente recauda unos ciento ochenta millónes aproximadamente ustedes

en la presentación de enmiendas iba a sacar las tenazas e iba a recortar cuánto lo voy a soltar a voleo porque también ha hecho usted a voleo su propuesta fiscal dos mil millónes de euros tres mil millónes de euros no me importa es que

tal y como decía montoro por la propuesta fiscal no suya sino de casado

ambas crecen salud lo hace en treinta y cuatro coma tres millónes de euros y educación lo hace seis coma dos millónes de euros con lo que mandan un mensaje nítido a la ciudadanía es que y es que su propuesta fiscal y su propuesta de enmiendas a este presupuesto es un chiste no es serio no es serio

una apuesta ideológica absolutamente respetable y esta sigue realista lo dicen ustedes vamos a recortar

las delegaciones la rgi pero luego empiezan con

en partidas como prensa revista libros y otras publicaciones

locomoción y gastos de estancia reuniones conferencias y cursos gastos de protocolo comunicación institucional drástica reducción en vehículos institucionales

lakua recortándole un millón de euros servicios generales de todos los departamentos como usted diría como usted acuñó

a debatir la regla de gasto demagogia política y fiscal la suya señor damborenea entiende el pp que el año que viene los altos cargos y técnicos del gobierno vasco no van a acudir a ninguna conferencia no van a publicar ninguna guía

no ya a papeles a papel impreso a redactarlo a boli porque es que tampoco van a ver

impresora demagogia demagogia política y fiscal mentirosa la que usted ha hecho hoy esto no es ni adelgazar la administración ni es una propuesta liberal ni es nada es una broma si quieren menos estado

dejar es a la mano liberal redactar la propuesta fiscal y a la mano democristiana redactar las enmiendas porque es que no casan y lo han hecho en apenas cinco meses si son ustedes liberales para recortar impuestos después hay que ser valiente hay que ser valiente y en las enmiendas hay que poner oiga pues vamos a recortar la mitad en educación o en salud sean valientes

háganlo pero con coherencia esta mañana escuchábamos

es decir en el año dos mil dieciocho ya sé que me va a decir gobernaba el partido socialista me es igual porque no voy a eso no voy al hecho en sí

o su portavoz esta mañana que es que cuando ha dicho

de salud o de educación yo entiendo que el presidente de andalucía ya habrá hecho una limpia en dos años de gobierno

en andalucía según lo podría decir usted bueno pues ha dicho que va a recortar de salud y de educación

horrela dela este gobierno prefiere asentar su acción de gobierno en principio mucho más sólidos como la equidad la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad de los presupuestos no solo en la plasmación de un proyecto que empieza en enero

sino que juega con un horizonte mucho más lejano y el hecho de que en cuatro años hayamos sido capaces de

y con aquellos que se consideran muy de izquierdas no es un demérito de quien se considera

que compartimos un modelo de sociedad en su modelo de sociedad señor damborenea

que está en el ideario y en el discurso pero que no ha ejemplificado

la sociedad vasca va a valorar con mejor nota

que valoran como muy buena o buena la sanidad vasca va a valorar mejor la sanidad vasca el metro de bilbao va a llegar va a estar más limpio el tranvía de

es atractivo su modelo de país la sociedad de que esto funciona entonces hacer oposición y plantear una revolución

pues no es atractivo y no es atractivo ni tan siquiera para usted que no se atreve a hacer los recortes que su propuesta fiscal demandaría están sus obsesiones y después están sus obsesiones como son la rgi y aquí la verdad es que el tema indigna un poco porque esta idea que usted traslada de que con setecientos euros se vive fenomenal y sin trabajar y además cobrando en negro cuando se sabe que el fraude de menos

esto de estigmatizar pues es un poquito indignante porque mire ni usted ni yo

hemos tenido vidas bueno nos hemos tenido que esforzar en los estudios en cualquier

entonces hay que empatizar un poquitín porque hay gente que no lo ha tenido tan fácil en esta vida y es una última red de subsistencia

y no las subvenciones nominativas vergonzantes y clientelares que ustedes proponen cada vez que les dan

podríamos tener la coincidencia de que tiene que haber un ascensor social potente

con un ecosistema económico donde las ideas germinen donde a los empresarios les vaya bien donde ganen dinero después

pero de ahí a criticar que todos los males provienen

hay un trecho la rgi es una última red de subsistencia necesaria

no se vaya a la calle y viva debajo de un puente las cosas son así de sencillas habla usted después del canon del agua un tema

once mil setecientos setenta y cuatro millónes de euros mire el canon del agua otra mentira que deslizan ustedes va a subir en doscientos treinta y tres por ciento la factura del agua

el ámbito doméstico no paga nada no paga nada matemáticamente si no paga nada y pagas un euro

yo no sé de dónde lo han sacado lo debatiremos en todo caso el domingo

después está el tema de adostuz y aquí hay que ser honestos no se puede decir a la vez

que sufraga prácticamente todos los chiringuitos todo el gerifalte que es la administración vasca y a la vez decir

tienen derecho a percibir algo que no esperaban

que su gobierno anuló y que este gobierno sorteó y terminó pagando sí sorteó y terminó pagando no hay que tratar

a la ciudadanía como niños pequeños lo cierto es que en aquellos años había

temblando porque tenían a su empresa o en quiebra o en una situación complicada

hubo que distribuir los esfuerzos hubo que distribuir los esfuerzos en este ámbito

con elkarrekin podemos habrá que debatirlo a partir del año que viene pero el enfoque que hay que darle es mirar a futuro

aún queda un punto que se pueda recuperar itzarri en fin ahí hay varios

señora corcuera bueno entiendo que esté dolida pero usted entiéndame a mí

y el que nos ha incumplido evidentemente es el partido nacionalista vasco ahora no me diga que disfrazo la enmienda a la totalidad disfrazamos la enmienda y que ustedes actúan sin mirar a las urnas porque le voy a recordar que el pacto fiscal que hicimos

se dejaba porque era para el veinte porque se dejaba para después de las elecciones municipales y forales porque ustedes

por eso se dejaba para después de esas elecciones y por eso era para el veinte porque después

hace ya seis meses estaba el plazo y el tiempo necesario para hacer la reforma para el veinte y ahora me viene usted diciendo poco más o menos que también estamos en año electoral y tampoco toca o sea que no me diga que aquí no están mirando a las urnas porque

hasta en los pactos lo hacen mirando a las urnas a ver nosotros no estamos felices por votar hoy vamos a votar que sí por votar que sí a devolver estos presupuestos al gobierno vasco

entre otras cosas porque son unos presupuestos que son malos para los vascos también para nosotros que también somos vascos

no estamos nada felices y menos viendo la deriva de este gobierno a todos los niveles en el económico en el político y en el social

y qué pasa usted no conoce jetas autóctonos o qué a ver cuando yo estoy diciendo que el fraude que hay yo no digo que lo hagan unos u otros a ver

autóctonos de hecho yo conozco varios autóctonos

y me dice se ha pacificado la educación concertada

uno de los puntos era que la subida de la concertada para el año veinte era cero era cero la previsión del proyecto de ley que nos trajo el señor azpiazu a este parlamento era la subida de sueldos de los profesores y profesoras de la concertada eso es lo que trajeron ustedes aquí el año pasado por estas fechas por estas fechas y en febrero en febrero que les dio mucha vergüenza lo equipararon a los funcionarios y

evidentemente a ver las partidas nominales señor arruabarrena en la prórroga presupuestaria no se pactan

la ley de prórroga establece qué partidas hay que

ley presupuestaria que regula la prórroga y verá hombre si usted considera que el club zuzenak

o que el baloncesto femenino sean clientelares del pp argazki araberri pues no lo sé no sé si son clientelares o no estaría encantado de que lo sean verdad

estaré encantado de que sean clientelares del partido popular no me consta no me consta pero en fin no tendría ningún inconveniente

sino por la norma presupuestaria que conoce muy bien el señor azpiazu que la ha incumplido también

y luego usted me dice vamos a ver si dejamos de hacer demagogia oiga

usted es un experto a ver reciente pero experto ha llegado recientemente pero

usted pretende o sea nuestra propuesta fiscal

eso es hacerse trampas en el solitario eso es hacerse trampas por qué no han querido pactar con nosotros el ingreso y el gasto ya verá cómo cuadraba

en el diecisiete y en el dieciocho pero ustedes se han negado se han negado a revisar el ingreso

y me dice que el sistema informático oiga sabe usted cuánto dineral nos gastamos en sistema informático

usted la corama no la conoció usted igual sí estudio

para ver el sector público tropecientos mil folios así todas las empresas entes a ver cómo estaban cuál sobraba salió que había una que se había quedado sin objeto social le

le cambiamos el objeto social se llamaba ejie se le cambia el objeto social

más de cuarenta o cincuenta millónes de euros y luego además cada departamento se gasta en informática una barbaridad

me dice que nuestros compañeros recortan oiga nosotros también hemos hecho enmiendas

en educación y en salud gasto corriente inútil a usted le molesta mucho las enmiendas en compras de libros en viajes en publicidad las que hacemos no si usted mirara la ejecución del presupuesto vería que la mayoría de ellas se ejecutan poco o nada y que ese dinero al final el gobierno cada departamento se lo gasta

en flores en flores se lo gasta en flores y por lo tanto se puede recortar de hecho en algunas de ellas

lo cual quiere decir que todavía se pueden recortar más porque si el gobierno vasco ya las recorta de motu propio haciendo casos a enmiendas nuestras del año pasado como nos ha pasado en educación

revise usted nuestras enmiendas del año pasado en educación y vea las partidas que ha traído el gobierno

esto de que alguien sepa cuánto le están defraudando me parece para nota

porque sabiendo que nos defraudan el dos por ciento y quién nos defrauda no sé por qué no estamos en el cero

porque lo ha dicho la consejera conoce a todos los defraudadores los conoce nosotros llevamos años pidiendo que se inspección esto bien y a mí no me hable usted de que hay que practicar con los menos favorecidos la ley que tenemos hoy la aprobamos nosotros

que lo sepa nosotros con aquellos señores no ustedes que se abstuvieron y sí

para proteger a los más desfavorecidos pero no para que nos hagan trampas por qué defienden ustedes que se puede hacer trampas un dos por ciento

y fiscalmente no porque yo no defiendo que haya defraudación fiscal ni si es mucha o poca

entiendo que el dinero público hay que controlarlo todo ello y

que para vida acomodada los del pnv durante estos treinta año

a ver ustedes van a gravar la toma del agua el consumo del agua y ahora va y me lo cuenta y me dice que eso es ecológicamente lo mejor

y el despilfarro que lo pague quién el responsable

eso no es muy ecologista me habla de adostuz y

es poco dinero lo que planteamos en nuestras enmiendas a este presupuesto

o quebramos el gobierno con nuestras enmiendas qué hacemos porque también hemos planteado

que las aes las ayudas de emergencia social sean partida ampliable por ejemplo por ponerle un ejemplo

y la paga de navidad oiga usted es para nota sí sí el gobierno de rajoy

sabe usted cuál fue el último gobierno en toda españa que devolvió la paga de navidad a los funcionarios

el suyo el suyo este es más este gobierno el último en devolver la extra de navidad a los funcionarios fue el gobierno vasco el último y encima pidiendo en madrid que en la ley de presupuestos se ponga que todavía no toque

lo cual también es para nota por lo tanto

yo no intente hacerse trampas en el solitario no me pide aquí que traiga un presupuesto alternativo con el ingreso y con el gasto con el presupuesto que ustedes nos han traído nosotros hemos presentado un presupuesto alternativo valórelo en las cifras que usted quiera valore adostuz como usted quiera

y valore las demás enmiendas al texto articulado en las cuantías que ustedes quieran

podían aprobar alguna eskerrik asko damborenea jauna

bueno vamos a ver señor damborenea mire rechazamos

todos ellos los que están incluidos en su enmienda a la totalidad ninguno de ellos es cierto y no por mucho repetir una mentira se hace verdad

lo mire por donde lo mire la cuestión de la fiscalidad no toca hasta dos mil veinte usted lo sabe usted estuvo en la firma otra cosa es que no quiera

en dos mil veinte se tomarán las decisiones oportunas hasta dos mil veinte no toca y eso es lo que usted firmó

no seguían ustedes el pacto que hicieron en el año dos mil diecisiete con el gobierno vasco no seguían ustedes el pacto que tenían

confirman ustedes una cosa y luego no le hacen el seguimiento

su enmienda a la totalidad es un calco un calco de la de dos mil diecinueve

solo siete parrafitos nuevos tan solo han adaptado algún dato incluso mal adaptado las ayudas a las familias han crecido han pasado de cuarenta y seis millónes en el año dos mil diecisiete

en la cuestión de familia el gobierno vasco está actuando ante el problema demográfico está el cuarto plan interinstitucional de apoyo a las familias que incluyen abanico además de treinta y cinco acciones en esta materia que se están desarrollando y llevando a cabo

como las mejores normativas y las más avanzadas a nivel de europa el pacto vasco por las familias y la infancia también es relevante y también lo tenemos en euskadi

que además de las iniciativas que ya están en marcha se van a incorporar una batería de nuevas actuaciones

respecto a la justicia gratuita que también usted la menciona en su enmienda a la totalidad es falso el incumplimiento del acuerdo sobre justicia gratuita es falso

un mal corta y pega el decreto elaborado en concurso con los colegios de abogacía de euskadi ha recibido además un premio

los módulos de justicia gratuita para delitos de violencia contra las mujeres se han incrementado un diez por ciento se están aplicando con absoluto rigor los nuevos módulos se está trabajando en la mejora de las instalaciones de los juzgados de violencia sobre la mujer

respecto a la obligación legal de ejecutar subvenciones nominativas prorrogadas bueno ya hemos hablado hasta la saciedad hemos estado aquí en un pleno les hemos demostrado otra cosa es que no quieran verlo les hemos demostrado

esas subvenciones nominativas que van en la prórroga presupuestaria y va a criterio de los departamentos si coinciden o no con sus políticas no porque estén hay que ejecutarlas no porque estén hay que ejecutarlas y dígaselo a su grupo porque insisten insisten entonces no lo van a conseguir pueden ustedes seguir errando

hay una primera premisa falsa que no se lo he comentado antes pero lo hago ahora el presupuesto dos mil veinte

no es verdad que sea inferior al ejecutado en dos mil dieciocho señor damborenea no es verdad y lo puedo decir con aire más compechano no es verdad pero es que da igual usted insiste insiste mire en disposiciones de gasto en el año dos mil dieciocho se ejecutaron once mil cuatrocientos sesenta y cuatro millónes de euros le recuerdo presupuesto dos mil veinte hamaika mila zazpiehun eta hirurogeita hamalau frente hamaika mila laurehun eta hirurogeita lau dónde es menor oiga dónde es menor ya está bien con la broma

nos dicen a nosotros que gastamos más en gasto corriente y ustedes van con sus enmiendas

hay más inversión hay más inversión en el año dos mil veinte que en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho de ochocientos treinta y siete millónes en dos mil diecisiete y novecientos veintitrés mil novecientos veintitrés millónes en dos mil dieciocho pasamos

eso son datos esos son realidades y son datos ciertos aunque a usted no le guste no hay ningún olvido en la inversión pública

se terminó en un noventa y siete coma dos por ciento del presupuesto

este es uno hay otro usted erre que erre con el finkatuz y por qué tiene que ser

es el otro los incrementos de créditos para los módulos del sistema educativo siguen ustedes yo entiendo que igual bueno voy a ser suave siguen errando no no es así en el texto articulado

de los módulos educativos incluido la concertada en temas de investigación e innovación este gobierno y en economía social que ha incrementado un cincuenta y seis por ciento sus partidas saben que no lo ha dejado de lado en investigación desarrollo e innovación saben ustedes que se ha incrementado más del cinco por ciento que había en el acuerdo

y termino la renta de garantía de ingresos usted decía que conocía algunos jetas que se dedicaban a esto del fraude fraude lo hay también hay fiscal hay fraude social pero también hay fraude fiscal

que hay un porcentaje de fraude fiscal equis conoce usted

y mire a mí lo que me parece muy irritante y realmente que no se puede pasar

un discurso absolutamente una intervención absolutamente xenófoba sectaria igual igual que la que hacía el señor maroto

es cobrar sobresueldos cuando uno no está percibiendo la renta de garantía de ingresos eso sí que es ser jeta eso sí que es ser jeta

presenta unos presupuestos responsables justos y redistributivos nada más y gracias eskerrik asko corcuera andrea

eskerrik asko bai bueno empiezo con el final de la señora corcuera

xenófoba porque usted ha dicho y lo he apuntado

los extranjeros son los más preparados lo ha dicho con sorna los que más títulos tienen

los que tenemos acceso a esta tribuna tenemos que hablar con mucho cuidado

apuntadas con antelación porque son faltas a la verdad que vienen

mentiras que venían en su enmienda a la totalidad y otras las he apuntado mientras hablaba usted

tanto en su enmienda a la totalidad como en su intervención de hoy la primera las subvenciones nominativas son de obligado cumplimiento es mentira tiene que mediar hombre tiene que mediar una acción

para que se ejecuten la segunda hablaba de la concertada antes no lo he comentado porque se me ha pasado se subió en febrero

por ciento y la subida de los sueldos de los que trabajan en la concertada ha sido la misma este año que los que trabajan en la empresa en la función pública la tercera esto lo dicen ya no lo ha dicho usted en su intervención lo dicen ustedes en la enmienda a la totalidad que el presupuesto ejecutado de dos mil dieciocho es mayor que el presupuesto

el gobierno mandó a esta cámara y uno va a los datos

y tiene ejecución del presupuesto de gastos diciembre de dos mil dieciocho once mil cuatrocientos sesenta y cuatro

es decir unos doscientos y pico trescientos millónes de euros por debajo el presupuesto ejecutado del dieciocho la cuarta dicen que las políticas

en las partidas ejecutadas de nuevo nos vamos a los datos y tenemos

la podemos la podríamos visualizar fácilmente en dos mil cuatro eran cuarenta y seis millónes los que se ofrecían como ayudas económicas a las familias con hijos e hijas y en el veinte están previstas ochenta millónes casi duplica casi duplica y además el incremento es

más dice usted se incrementa ochenta y nueve millónes de euros el aumento de gasto corriente solamente son nueve solamente nueve de ellos son para aumento

después en el pacto del agua lo del pacto del agua lo cierto es que lo tengo bastante fresco porque voy a ser yo el que lo debata con su compañera

hay tres patas la captación doméstica la captación industrial y la agropecuaria para la agropecuaria

pero no se estaba cobrando se va a cobrar por captación y tiene sentido hacerlo así ese dato de incremento en la tarifa del doscientos treinta y tres por ciento se lo han sacado ustedes

es falso hablan la señora llanos sabrá de esto hablan de que desde el dos mil dieciocho el decreto está congelado cosa que es incierta cada año se destina

la tabla departamento por departamento la media es de más del noventa y siete por ciento el departamento que menos ejecuta es del ochenta y nueve por ciento y efectivamente la línea que menos ejecuta es del tren de alta velocidad

y las ejecuciones en el tav han sido bajas siempre y el décimo

de la paga extra mire la paga extra el gobierno vasco estuvo en disposición de hacerlo la primera

no se lo permitió nosotros entendemos que una posición política sólida siempre renta más que una débil

xenofóbico que usted muestra en sus declaraciones desde luego no le hace ningún favor

egun on guztioi la segunda mitad del año dos mil diecinueve está siendo prodiga en señales de un cambio en el ciclo en la economía global

a una desaceleración de la economía si no a un golpe aún mayor

las previsiones para las principales economías por nuestra parte el crecimiento del dos coma dos por ciento previsto por el gobierno vasco para dos mil diecinueve es la cifra más baja en nuestra comunidad desde finales de dos mil catorce y el pronóstico para el año próximo

al dos por ciento estas cifras sin indicar una recesión inminente sí señalan una clara tendencia

la desaceleración del crecimiento económico tras la gran recesión esa desaceleración global ya está en curso

más compleja que se ve protagonizada por cuatro vectores fundamentales que definen la evolución estructural de la situación dos crisis una revolución y una disrupción

la revolución la feminista la disrupción la tecnológica

no por curiosidad intelectual sino por la constatación de que estos fenómenos globales determinan por completo la realidad también nuestra realidad

cualquier análisis que quiera ser efectivo empezaremos por la crisis ecológica

de civilización en los términos en los que actualmente la entendemos la amenaza que la acción humana ha generado sobre el equilibrio medioambiental del planeta obliga a una acción inmediata

y reconducir el modelo productivo a parámetros compatibles con la supervivencia de la biodiversidad es una batalla que no se va a ganar desde la propaganda sino desde las medidas claras contundentes y efectivas ya que al clima no se le puede seducir con promesas electorales la segunda gran crisis es la de la

la lucha de la clase trabajadora y la existencia de un contra modelo aparentemente factible hizo que durante las décadas posteriores a la segunda guerra mundial se produjera un sostenido

acompañado de un reparto inéditamente equilibrado de los beneficios la derrota del bloque socialista en la guerra fría y la posterior hegemonía neoliberal han revertido este reparto y volvemos a presenciar una brutal concentración de la riqueza que se traduce en un crecimiento exponencial del número de multimillónarios y de su poder

y se incrementa la exclusión social las sociedades se polarizan

la democracia se desdibuja ante los poderes en la sombra y las élites imponen su agenda a una clase política sometida bajadas de salarios bajadas de impuestos para los ricos

a cargo de la presión a las clases más bajas el malestar imperante hace que se fortalezcan los discursos que enfrentan a los pobres entre sí amparados por un poder económico

como antídoto frente a un análisis que proponga revertir el injusto reparto de la riqueza

el fenómeno más importante que nos ha tocado vivir a quienes hoy estamos vivos el cambio socio cultural más profundo de la historia de la humanidad porque afecta al estatus de la mitad de sus componentes que ha tomado conciencia de su igualdad absoluta y de la necesidad de aplicar esa igualdad a todas las facetas de la vida esta lucha empodera a las mujeres

a renunciar a privilegios adquiridos pero obliga a todas a hacer un esfuerzo de detección

de las estructuras sociales mentales económicas y de cualquier otra índole generadas bajo el marco del patriarcado una revolución que aún debe afrontar muchas batallas hasta alcanzar el último y radical objetivo de la igualdad entre todas las personas y finalmente en el ámbito de la tecnología solo cabe señalar aquí que afrontamos un futuro inminente en el que los cambios tecnológicos serán tan profundos que alterarán los procesos productivos

peligros y desafíos de una dimensión nunca vista la inteligencia artificial la

cambiarán nuestra manera de entender la economía y la sociedad de entender el mundo

nos afectan tiene una traducción inmediata y tenemos que tomar decisiones en relación a esos fenómenos aquí y ahora también en el marco del debate presupuestario porque nos interpelan a escoger nuestro lugar ante las dicotomías que nos plantean lucharemos contra el cambio climático y por la transición ecológica

o en esa forma light de negacionismo que consiste en aceptar el problema pero negarse a implementar las soluciones lucharemos contra la desigualdad o contribuiremos a ella vamos a subir los salarios a las personas trabajadoras

o vamos a hacer la ola a confebask aunque aplica a rajatabla la reforma elaborada para buscar la devaluación interna es decir para bajar los salarios subimos los impuestos a los que más tienen o regalamos a los ricos trescientos millónes de euros anuales mediante la liquidación de los impuestos de sucesiones y patrimonios que defienden ahora los diputados generales de la derecha

para hacer como que hacemos construimos una sociedad y una economía del conocimiento o tratamos de seguir viviendo de las rentas

y nos pasamos al que inventen ellos como somos vascos que inventen ellos pues no es que se sucedan los cambios de paradigma sino que el cambio es el nuevo paradigma

de resiliencia de prospectiva y proactividad la situación exige

capacidad de formulación de estrategias con visión a medio y largo plazo

implicados en dinámicas compartidas exige en definitiva liderazgo una altitud diametralmente opuesta a la de un gobierno vasco

en negar los problemas mientras puede a atribuir a otros la responsabilidad o alegar que en españa están peor cuando los problemas son ya innegables y en aparentar hacer cosas en lugar

machado handiak idatzi zuenez monotonía de lluvia tras los cristales

kokatzen du no solo hay malos resultados en la comparación con el estado hay muchos otros indicadores que se iluminen con luz roja el gobierno subraya ufano hoy mismo

que la tasa de desempleo de la cav está en el nueve coma dos por ciento pero ese nueve coma dos por ciento es una tasa muy alta para la unión europea muy alta la unión europea tiene una media de desempleo del seis coma tres una media solo grecia italia y españa

perdón nueve coma dos por ciento vasco peor aún peor aún mientras en la unión europea la tasa de paro actual es la más baja de la historia

triplicamos el mejor registro que logramos en dos mil siete con un tres coma uno y ello bueno luego nos dicen que cumplido el objetivo de legislatura menudo objetivo

del mercado laboral en dos mil dieciocho se firmaron más de un millón de contratos pero nueve de cada diez fueron temporales la mitad con una duración menor o igual a un mes

y un tercio un contrato temporal el doce coma tres por ciento de la población que está trabajando se encuentra en una situación de exclusión y en la cav el veinte por ciento de los perceptores de la rgi son personas trabajadoras a los que evidentemente a ofertar un trabajo como salida a su situación porque trabajo ya tienen lo que no tienen es un salario suficiente todos los indicadores negativos paro pobreza precariedad temporalidad se agravan para las mujeres que tienen una renta personal un veintitrés coma cinco por ciento menor diferencia que se multiplica entre las pensionistas según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales

en riesgo de pobreza un catorce por ciento más que en dos mil dieciséis a pesar de que son años de crecimiento y un cuarenta y uno por ciento más que en dos mil ocho

hizo su casita de paja otro de madera y el tercero de ladrillos algo así ha sucedido con el impacto de la crisis en las diferentes economías de los diferentes estados todos han sentido el soplido del lobo el huracán de la crisis

ha sido diferente en función de la solidez de las estructuras económicas preexistentes las economías más robustas tras el ciclón de dos mil ocho dos mil nueve

el estado español no lo hizo hasta dos mil diecisiete su casita económica era de paja

lo peor es que ahora estamos reuniendo los maderos para reconstruir una casa de tablas y palitos

para repensar el país y hacer apuestas por fortalecer nuestro modelo avanzando hacia un tejido productivo basado la industria de vanguardia y el conocimiento que no deje atrás personas ni comarcas pero para eso hacía falta un liderazgo político que se pusiera a ello y no ha sido así

y al gobierno le parece bien tenemos un gobierno que paga más a sus policías que a sus científicas o a sus profesores

al personal investigador que mantiene a su universidad pública en mínimos

con beca de miseria para que sean a la vez doctorandos y camareros tenemos alquileres más altos que muchos salarios hemos bajado a la tercera división europea de innovación

que de alemania estamos a la cabeza de pérdida de poder adquisitivo de los salarios en el estado tenemos un país en el que sus gobernantes se esfuerzan más

denominó fabricar el consentimiento que en la resolución real de los problemas

debidamente magnificados busca generar la imagen del euskadi va bien en este país

mientras que la mochila que colocamos sus mayores en la espalda es la mochila amarilla de glovo

mozorro moreaz beste eztabaidetan hitz egiteko aukera izango dugu azter dezagun orain mozorro berdea el veinte por ciento del supuesto paquete verde se cae de saque

que son los que se dedican al tav en contra de lo que la consejera

y más allá de la discusión de si estas inversiones son favorables al clima o no lo que es claro es que no son inversiones a computar al gobierno vasco en todo caso al gobierno de madrid y si se computará al gobierno vasco habría que convenir en que ha habido en esta legislatura presupuestos mucho más ambiciosos en dar respuesta al cambio climático como por ejemplo en dos mil diecisiete

no es normal incluir tampoco como partida contra el cambio climático un plan renove que ampare la compra de vehículos de gasoil y gasolina y hay otras muchas partidas de dudosísimo encaje como las destinadas a organizar

de la sostenibilidad no es de recibo incluir partidas para la explotación de hidrocarburos como las dedicadas a sesa no es presupuesto verde

que ellos mismos han llamado adaptación al cambio climático llama mucho la atención que solamente uno coma cinco millónes son para una actuación real que es una obra de ura en gasteiz que tenía que estar hecha ya por cierto el resto

políticos discutiendo sobre el cambio climático muchos la conocerán

porque ha consistido en avalar un recorte de los fondos destinados a financiar la transición energética de las administraciones podemos no ha logrado cien millónes para financiar la sostenibilidad energética de las administraciones públicas lo que podemos ha logrado es que el gobierno pueda posponer el cumplimiento de un mandato legalmente obligatorio han vuelto a aplicar una versión retorcida

de las administraciones no voy a decir que ustedes hayan aplicado el pase foral porque este concepto

porque se pasan por el forro lo que recoge la ley desactivan otra vez como han hecho con la rgi vía ley de presupuestos las mejoras conquistadas en la lucha por la ecología e inaplican un artículo de la ley

de un instrumento financiero que se constituirá que se constituirá con cien millónes en este ejercicio y no en dos mil veintisiete están ayudando al gobierno a hacer mal las cosas en el ámbito de la lucha contra el cambio climático están apoyando su estrategia de convertir en una cuestión

de supervivencia para el planeta legitiman el falso discurso verde del gobierno y facilitan que eluda sus responsabilidades y ya que hablamos de recortes auspiciados por podemos

imaginen que tienen un convenio laboral en vigor que recoge una subida salarial del cinco por ciento la empresa

cómo considerarían esa decisión una subida a celebrar aunque no sea todo lo acordado o un recorte ilegítimo de sus derechos que requiere una respuesta movilizadora

la respuesta válida es la primera el recorte de los derechos recogidos en la ley de garantía de ingresos aprobado por el pnv

no corresponde a un momento de tensión presupuestaria o de estrechez económica sino a una decisión ideológica

porque cree que se les da mucho y esa es la clave ustedes creen que se les da porque estamos ante una lógica limosnera y no una lógica de derechos la sociedad la sociedad conquistó tras una lucha popular culminada

el derecho a un ingreso mínimo garantizado no subastado garantizado para todas las personas y eso a este gobierno le parece un exceso han transmutado un derecho obscena subasta anual en la que parece que los ingresos de las personas más necesitadas se pueden referenciar no a sus necesidades básicas sino a la política de alianzas presupuestarias

podemos ha firmado un mal acuerdo con el pnv no por ser acuerdo ni por ser con el pnv sino porque es malo avala los presupuestos a cambio de cien millónes en dos años porque los otros cien millónes como ya ha quedado demostrado son los de obligado cumplimiento de la ley de sostenibilidad energética

al pnv para el resto de la legislatura es una capacidad negociadora inferior a la del partido popular que se llevaba cuarenta millónes pero además una reforma fiscal de su gusto

pero eso no es lo peor lo peor es que podemos para justificar una decisión política

pero para justificar sus cambios está lavando la cara al pnv están colaborando en la legitimación de las políticas del pnv

que nadie ve idoia mendia zanjó el debate con rotundidad cuando le preguntaron por este supuesto giro que por cierto el periodista en la propia pregunta calificaba de engaño the idoia mendia deceit literalki ese es el

el programa de gobierno es claro me llama la atención que los medios de comunicación hayan comprado una cosa tan facilona todo

los presupuestos son continuistas pues bueno habló idoia mendia

qué ha cambiado los presupuestos o podemos no creo que haya nadie en esta cámara ni en todo el país de dude cuál es la respuesta aunque algunos carezcan de la madurez política de reconocerlo por la irresponsabilidad de podemos al otorgar el label verde y morado al pnv será más difícil construir una crítica y una práctica política

patriarcales y ecocidas afortunadamente cada uno tiene la credibilidad que tiene y la izquierda vasca hemos hecho cosas

es un claro exponente de la visión cortoplacista e inercial del gobierno vasco

por encima de las políticas reales nos encontramos ante el mismo producto en distinto envoltorio

verdes morados y rojos para dirigirlo a un nuevo segmento de mercado

comprobamos que el producto es exactamente el mismo los ingredientes son los mismos y en la misma proporción no hemos regresado aún a la situación incluso con todas las carencias que también por supuesto que existían en aquel momento pero sí hemos desaprovechado cinco años de fuerte crecimiento global para cerrar las heridas socioeconómicas

el dos mil veinte necesitamos sí necesitamos un escudo para afrontar los tiempos que vienen un escudo que proteja a la gente pero no un escudo de palabras sino un escudo de recursos económicos y de políticas decididas necesitamos un sistema de servicios públicos que suponga una red de seguridad compartida que garantice unos derechos y unos recursos materiales básicos al conjunto de la población

que permita a cada cual desplegar sus capacidades independientemente de su estatus socioeconómico necesitamos ambiciosas políticas de transición ecológica

necesitamos que las instituciones públicas multipliquen sus esfuerzos por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres necesitamos un impulso al sistema productivo para que nuestra industria pueda hacer frente al colosal proceso

la globalización y el desarrollo tecnológico a través de la lucha social de la movilización de la denuncia y de la propuesta y también desde la acción política institucional

que quiere cambios y futuro se va imponiendo ahora es necesario poner números a estas letras

no da ese paso y se nos presenta como un clon de presupuestos anteriores por eso décimos no a estos presupuestos porque nosotros y nosotras no tragamos con el marketing ni los recortes queremos compromisos reales

la firmeza del presente es la semilla de cambios reales en el futuro eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna aurkako txandan

miren tengo que reconocer que el grupo socialista tenía dudas en cuanto al turno para intervenir en el debate de la enmienda a la totalidad que nos presenta euskal herria bildu

de voto o en el turno en contra porque leyendo el texto en el que se justifica la devolución de los presupuestos entendíamos

no era los presupuestos del gobierno que compartimos nacionalistas y los socialistas vascos sino que se trata de una enmienda de totalidad a parte

y leyendo el texto lo que ustedes presentan también es una enmienda a la totalidad

porque se nos explica cuánto mejor sería euskadi con una república vasca

y como estos asuntos forman parte de nuestros análisis en la ponencia de autogobierno y como en los presupuestos no hay un solo euro que tenga que ver con este asunto

el voto sin más pero no los socialistas vamos a justificar una vez más la necesidad de que estas cuentas salgan adelante para fortalecer el programa de gobierno

y vamos a rechazar su enmienda de devolución de los presupuestos para fortalecer uno de los bienes más preciados más apreciados también por la ciudadanía como es la estabilidad

nuestros derechos y nos hacen progresar juntos a nacionalistas y a no nacionalistas y quiero empezar por una frase recogida en la enmienda que compartimos porque dice euskal herria bildu que todo esfuerzo queda cojo a menudo se pierde coherencia y eficacia y nos quedamos sin asideros para abordar las lagunas y situaciones injustas existentes es verdad cuando desde cada partido nos esforzamos en convencer a la gente para que nos vote

no nos concede en las urnas mayorías absolutas pues la ciudadanía nos obliga a acordar y cuando acordamos tenemos que ver partes de razón en los demás

poder avanzar cuando los socialistas vascos pactamos asumimos que no podemos llevar todo nuestro programa adelante y lo que hacemos es orientar las políticas públicas lo más cerca posible a nuestras propuestas aunque esto suponga avanzar de forma más lenta

hacia un reforzamiento de lo público para avanzar en cohesión social y hasta tal punto que hoy aquí casi todo el mundo se define como socialdemócrata

como se va avanzando y eso se llama principio de realidad y en esa expresión que he citado de la enmienda de euskal herria bildu ustedes se delatan todo lo que no sea suyo todo lo que no sea guardar las esencias todo lo que suponga esfuerzo por acordar según ustedes deriva

eso es lo que le pasa a euskal herria bildu y lo que no nos pasa a los socialistas vascos porque a nosotros pactar con otros grupos parlamentarios no nos quita ni medio gramo de coherencia al contrario

nos permite mantener un hilo de complementariedad de las políticas en las que participamos

pelos en la gatera sí le quita coherencia porque euskal herria bildu ha decidido que solo es posible consensuar desde la máxima de que se les otorga la razón en todo o no hay acuerdo posible y pactar no quita eficacia a las políticas

pero sin duda es mucho más eficaz para la ciudadanía vasca pactar un presupuesto anual que se adapte a las necesidades urgencias y prioridades de esa ciudadanía que provocar una prórroga es más eficaz posibilitar la consecución de programas y acciones planificadas desde estrategias consensuadas consolidando políticas públicas impulsando la economía y creando empleo de calidad y profundizando en la cohesión social

a una prórroga presupuestaria es mucho más eficaz utilizar en servicios públicos los recursos económicos conseguidos gracias a una reforma fiscal

a no pactar ni los ingresos ni los gastos de un presupuesto

contar con más oportunidades de empleo que dejar varado a un país a la espera de que se haga lo que uno y solo uno quiere euskal herria bildu da muestras una vez más ante los hitos importantes vértigo que ya demostró el año pasado cuando sí se atrevió a hablar cuando tuvo la puerta abierta de la sede socialista la primera que se le abrió

cuando tuvo después al conjunto del gobierno para llevarlo a la práctica y cuando euskal herria bildu miró de repente el calendario electoral se ocupó de influir en titulares y se olvidó de influir en la vida de la gente el grupo socialista no puede más que compartir

la enorme preocupación por una desigualdad enquistada que necesita respuestas pero lo que no compartimos con ustedes son las posiciones que se adoptan ante las soluciones como la reforma de la renta de garantía de ingresos al querer dejarla varada en el cajón de los asuntos parlamentarios sin resolver compartimos la preocupación por los grandes riesgos e incertidumbres que nos acechan

donde no se ofrecen soluciones pero nuestra respuesta a ello desde euskadi son unos presupuestos para dos mil veinte con los que se actúa directamente la respuesta

ustedes ponen las vidas en el centro de la política no

nos hablan de una reforma fiscal sí y también lo compartimos

volveremos a esa cuestión pero es un desiderátum que luego no trasladan ustedes a sus enmiendas parciales hablan de subir el salario mínimo y también lo compartimos porque donde se pueda competencialmente se hará si hay un gobierno socialista en españa se hará pero donde no se puede competencialmente como no ha hecho bildu

no se hace y no se puede hacer ustedes lo saben y por mucho insistir y repetir esa cuestión no la van a hacer ustedes posible cuando no hay competencias

hablan de trabajar contra la precariedad laboral y pasan por alto que desde hace tres años hemos volcado todos los recursos de la inspección de trabajo en esa tarea

han regularizado sus contratos gracias a la acción dirigida por el departamento de trabajo

para una transición ecológica ante la emergencia climática y lo compartimos está en el programa de gobierno está en la dirección del departamento del señor arriola entre otros

para devolver los presupuestos cuando el camino normativo para hacerlo posible está ya en marcha y sus enmiendas parciales quedan además muy lejos cuantitativamente de avalar su enmienda a la totalidad hablan de arraigo de empresas y tenemos un recorrido ya compartido señor casanova con el diseño

y ese saben ustedes que es un objetivo que compartimos pero saben que eso es imposible

por eso propusimos los socialistas la pasada legislatura una subida progresiva de al menos el cinco por ciento anual y euskal herria bildu lo compartió y por eso es tan difícil de entender que se empeñen año a año en esas

a sí mismos pero en fin tengo la sensación de que ante ustedes es un esfuerzo bastante baldío intentar argumentar presupuestariamente

es una sensación que no se puede evitar cuando la enmienda a la totalidad se sostiene fuera de nuestro ámbito competencial o al menos sobre la reivindicación de la independencia como es el caso lo que tenemos claro los socialistas es que cuando votemos y rechacemos las enmiendas de totalidad a los presupuestos para dos mil veinte podremos decirle a la ciudadanía

que sostienen nuestros servicios públicos y nuestro modelo de protección social que sostienen los planes de empleo que ya diseñamos para toda la legislatura que se atienden los retos climáticos y que se consigue que la igualdad atraviese todas las políticas cuando pase este trámite para las últimas cuentas de esta legislatura

implicarse sin complejos en la gobernabilidad de euskadi

lanzados hace tres años todas las debilidades y calamidades anunciadas han quedado borradas por la realidad de los hechos y la realidad es que

estamos hoy mejor pertrechados para afrontar cualquier incertidumbre y por eso vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad que ha presentado euskal herria bildu gracias

casanova nos ha soltado un discurso desde la atalaya del observador privilegiado

prospectiva catarsis paradigma liderazgo histórico dogma neoliberal pero el poso que queda es que sigue

de la oposición en euskadi lo que ha hecho ha sido recopilar todos los lemas que pueblan las pancartas de euskadi y las han traído aquí pero a modo de lemas

para alguien que posiblemente sea posibilista como usted una negociación presupuestaria y decir bueno cómo le décimos que no al gobierno

al gobierno este año sin que suene repetitivo este

en aquel punto el partido popular y elkarrekin podemos salieron antes de la negociación y sintieron un cierto vértigo un cierto vértigo que terminó

prácticamente unos minutos antes de presentar la enmienda se retiraron retiraron su apoyo a los presupuestos y presentaron la enmienda a la totalidad no han tenido ninguna voluntad de acuerdo porque de haberla tenido hubieran retomado la negociación presupuestaria del año pasado donde quedaron a cuarenta

y este año que tenemos un tres por ciento más de posibilidad de gasto en gasto corriente porque íbamos a amortizar un poco menos de deuda podía haber usted dicho bueno pues vamos a cubrir esos cuarenta euros

para que alcancemos el acuerdo presupuestario del año pasado un acuerdo presupuestario que en fin que tampoco es de adalides del buen negociador porque

en los doscientos uno millónes de euros conseguidos en la valoración económica del acuerdo de la oferta que le hizo a bildu que es pública prácticamente un tercio de los

de los ciento cuarenta y dos millónes era en inversiones sostenibles es decir que solamente se iban a dar si la recaudación iba por encima de lo esperado por tanto

a una negociación presupuestaria diciendo algo así como que el gobierno

verde que han hecho greenwhashing haciéndonos creer que ustedes son una especie de aficionados a la política que se informa de la política por los dominicales deia y no ustedes tienen dieciocho parlamentarios no sé cuántos asesores para desgajar

del presupuesto y ver hacia dónde van su postura en estos presupuestos se describe en tres documentos la primera es la que presentó

presupuestos vascos del gobierno vasco en dos mil veinte ningún giro a la izquierda

y lo primero que llama la atención es la enorme distancia que hay

que es pintura verde morada puro marketing es lo que se observa

en sus enmiendas porque el ejercicio de presentar enmiendas es una especie

la poesía que se ve en sus directrices y otra es la prosa eta zuek

no han presentado ustedes ninguna enmienda cero enmiendas en este presupuesto y demandan dos cosas las cláusulas sociales que ustedes cuando estuvieron en navarra no aplicaron en la ley de contratación pública

no es una propuesta que haga el pnv es una propuesta que hace eh bildu no fue coherente cuando gobernaban en navarra

en la recuperación salarial y yo no sé si vivimos en países diferentes pero yo he seleccionado tres noticias de tres medios distintos para que no haya sesgo la primera es noticias de gipuzkoa de julio de dos mil diecisiete

en que la recuperación obliga a una subida de sueldos general mayo del dos mil dieciocho el lehendakari apela a subir los sueldos esto es

y la tercera es hace escasamente un mes la conferencia que dio el señor azpiazu

este ya existe y en el ámbito de los convenios colectivos ustedes saben que hay dos partes

y este partido y tampoco el gobierno se alinea en ninguna trinchera como hacen ustedes pero partimos desde un punto de vista de objetividad y de honestidad intelectual y en este sentido ya que ustedes le hacen tanto caso a ela

por qué quién ha jugado en este país a cuanto peor mejor quién ha jugado a romper las negociaciones

a este sindicato le solicitaría cierta reciprocidad txirotasunaren esparruan

casi la totalidad de lo que proponen este año como enmienda lo cual

su vértigo a pactar y en este ámbito yo que soy del pnv no soy del gobierno sí que puedo bueno sí que podemos sacar a relucir que el

al gobierno de rajoy para que se pospusiera el factor

congresistas en madrid después viene la industria vamos a ver a usted yo prácticamente desde que estoy

en este parlamento posiblemente desde antes ha hecho usted un discurso grandioso sobre la industria y sobre la intervención que tiene que tener el gobierno de la industria bueno pues ha propuesto doce millónes de euros

no hay más doce millónes de euros insiste usted que hay que comprar la naval de que la participación en euskaltel hay que subirlo

para tener alguien del gobierno en los consejos de administración por encima del tres o del cinco por ciento dependiendo de la empresa

importante y fuerte en todos los sectores estratégicos y ustedes proponen doce millónes de euros quedará pues no sé para comprar el diez por ciento de la empresa iguria de elorrio pero no mucho más no el mundo de hoy es cada día más complejo y

en la unión soviética esto se trata de hacer lo que he dicho antes lo que le he dicho antes al señor damborenea

les vaya bien el fondo finkatuz ez sin duda un paso adelante pero no va no tiene que ser el último ingurugiroaren proposamenean

simplificar los problemas y antagonizar al oponente político sino ofrecer soluciones que se puedan llevar a la práctica es fácil pero al segundo partido de euskadi se le debe solicitar

yo de verdad desearía a nuestro grupo desearía que se pudiera contar con ustedes en el futuro eskerrik asko

egun on berriro empezaré con la señora corcuera aunque he de reconocer que debatir sobre presupuestos con el partido socialista de euskadi es una experiencia un poco extraña no sí porque mire en el mundo animal hay una seria de migraciones que son conocidas no la mariposa monarca

los salmones pero yo creo que hay una que todos conocemos que es la del ñu del serengueti

no nos habremos dormido con esas imágenes de los ñus que pasan el río siempre hay un cocodrilo

en el ámbito político vasco hay una migración de las mismas dimensiones éticas que

que es la de socialista vasco cuando llega la época del debate presupuestario ustedes están ahí en sus praderas y entienda lo de animales sin ningún tipo de ánimo peyorativo animal político en el sentido aristotélico

ustedes escapan y pasan un par de meses en otros territorios desconocidos territorios del derecho a decidir del nuevo estatus de la gobernabilidad en madrid pero sobre presupuestos

vuelven y preguntar al pnv oye qué ha pasado qué ha pasado con estos hemos aprobado y vienen aquí y le mandan a usted o a la señora castelo con

y la fortaleza de un guerrero templario a defender lo que el pnv ha decidido y ustedes da igual arre que so pp pero

a por bildu venga oiga yo creo que mejor harían ustedes y ha mencionado el debate del año pasado

tocamos su puerta con la ingenua intención de que siendo ustedes un partido que se dice de izquierdas y entendiendo nosotros que las propuestas que planteábamos eran de izquierdas y que les deberían agradar tal y como nos reconocieron incluso en público que eran las propuestas interesantes pues entendíamos que íbamos a buscar un cómplice un cómplice en el sentido positivo de la palabra que íbamos a encontrar una complicidad en otro partido de izquierdas para hacer juntos presión los dos nacionalista vasco y que consiguiera que esos objetivos razonables y deseables desde una perspectiva de izquierda que teóricamente compartíamos saliera adelante

migraron y aparecieron como siempre tarde y después con los hechos ya consumados

porque me incluyo en la crítica cómo es posible que en este país los partidos autodenominados de izquierdas tengamos en esta cámara el cincuenta y uno por ciento de los votos

y en los presupuestos el psoe determine el cuatro y pico por ciento de sus tres departamentos porque

la izquierda tiene el cincuenta y uno por ciento de los votos en este país y el cinco por ciento

y sabemos que son absolutamente reinos de taifas reinos de taifas

en los cuales ustedes gestionan lo suyo y el pnv gestiona lo suyo también lo malo de traer

inbertituko dute berriak porque es un país serio porque la derecha no puede venir a inventarse cosas a una tribuna porque hay menos de comunicación porque hay opinión crítica porque no se puede tomar el pelo a la gente

y aplicando eso proporcionalmente comparando nuestros pib estaríamos hablando de trescientos millónes

por la oposición por insuficiente por los verdes por insuficiente y es una propuesta de la derecha alemana y equivaldría a incrementar en trescientos millónes nuevos y dedicados exclusivamente energética esa es la desproporción esa es la desproporción entre las palabras huecas y la voluntad de cumplir las cosas y nos dicen la señora tapia

dos mil treinta está alineada está alineada con la estrategia europea

un treinta y dos por ciento de renovables y aquí planteamos un veintiuno por ciento catorce producido y siete importado eso no es estar alineado

pero da igual da igual todo funciona para la propaganda todo funciona para la propaganda caricaturizan ustedes las pancartas yo aquí he dado unos datos que no creo que sean

que invirtamos menos de nuestro producto interior bruto en educación que la media europea que las recomendaciones europeas que lo que hacíamos hace

que haya problemas que haya precariedad en el mercado laboral que los sueldos bajen que nos adelanten otras comunidades no sé si todo eso cabría en una pancarta yo voy a hacer una apología de la pancarta porque la política no se reduce a la pancarta a la calle a la movilización no se reduce a eso la política es más que eso pero también es eso

lo que se hace en estas cuatro paredes porque si no fuera por una pancarta no tendríamos sanidad pública las mujeres no tendrían derecho a voto

no se trabajarían ocho horas aunque ahora quizás por falta de pancartas se trabaja mucho más que ocho horas si no fuera por la movilización de la gente y por la lucha de la gente

estamos orgullosos de estar en la pancarta pero también estamos aquí en la propuesta

a poner encima de la mesa esas propuestas y no voy a rebatir sus alusiones sobre las enmiendas

proposamen berberak eta renta de garantía de ingresos se ha rebajado la renta de garantía de ingresos y he puesto un ejemplo tampoco me rebaten lo que he dicho me rebaten lo que le gustaría que hubiera dicho lo que se inventan que he dicho o cosas que se han dicho o el documento de ela como si yo fuera de ela

le están recortando y si además se ha quitado la referenciación y ese es el recorte mayor más allá de un siete por ciento

se mide de forma relativa al bienestar y a los ingresos que tiene la sociedad

por tanto si queremos garantizar un ingreso a la ciudadanía de este país que les permita estar fuera de la pobreza ese ingreso tiene que estar

a algo y como el smi que era lo que estaba referenciado y ustedes vía ley de presupuestos se lo cargan le aplican también el pase forral a la ley de garantía de ingresos dos mil ocho como

entre lo que se percibe y lo que la ley dos mil ocho recibía es aún mayor que en años anteriores porque todos están haciendo recortes en la rgi están haciendo recortes en la rgi

a hacer la enmienda a podemos no no mire la enmienda a la totalidad más importante que se va a votar hoy no es la del partido popular ni la de euskal herria bildu

y eso puede estar bien o puede estar mal pero hoy desde luego es un punto de inflexión es un punto de inflexión que lo planteo desde la tristeza política y no se han hablado de elecciones porque

no sé parece que todo lo hacemos en clave electoral suele decirse aquello de que piensa el ladrón que todos son de su condición pero desde mi punto de vista estamos en una especie de isla de pascua electoral saben que la isla de pascua es el territorio más lejano

o años que estemos más lejos de una convoca electoral nosotros no hacemos esto por las secciones ni he traído ningún gráfico aquí como

con podemos en términos de competencia de que nos quiten votos ese gráfico estaría en su punto mínimo histórico a nosotros no nos preocupa que con este movimiento podemos nos pueda quitar espacio electoral al contrario al contrario

en exclusiva lo que nos preocupa es que se debiliten las posiciones ideológicas y la capacidad de la lucha de izquierda en este país porque para dar el timo de la estampita

billetes verdes morados y rojos pero también se necesita un gancho que le dé credibilidad alguien que diga es verdad lo que dice este señor hay que comprarle esos billetes que son billetes y ese es el triste papel que ustedes han jugado hoy gure ustez inertzian murgilduta gaude eta bai

sí vamos a ver gracias presidenta los cambios de calado que propone euskal herria bildu

han sido propuestas que se han debatido en esta cámara y que han concluido con acuerdos les guste más o les guste menos pero ustedes

con su inercia de presentar los mismos temas hayan sido acordados o no

no en todos sus términos euskal herria bildu tiene un verdadero problema con el tema de los pactos siempre plantea el todo o la nada y ocurrió en la negociación presupuestaria

renunciaron a trece acciones de calado en las políticas de empleo y a acordar un plan de inversiones financieramente sostenibles en el ámbito de la sanidad de la educación

eran esas inversiones financieramente sostenibles y renunciaron a ciento cuarenta y dos coma seis millónes de euros y nos abocaron a una prórroga presupuestaria y no estaba en aquellos acuerdos no estaba al menos en la negociación nunca se referenció el tema

ustedes sí que hicieron pase forral en aquel momento para la prórroga presupuestaria para los presupuestos del dos mil diecinueve que acabaron en prórroga presupuestaria

que con un importe de doscientos dos millónes de euros en enmiendas parciales para unos presupuestos del dos mil veinte no han planteado

ni una alternativa de modelo económico ni una alternativa de modelo político ni una alternativa de modelo social ni para euskadi ahora ni para euskadi en los tres años anteriores ustedes hablan de que los socialistas

claro es que se están pasando años y años en cuanto a los hitos importantes de euskadi en los que

año tras año ustedes no han participado nunca

de cuarenta años de autogobierno jamás han participado de lo que podemos considerar como importante para el avance de la sociedad vasca el año pasado

les esperamos hasta el último minuto antes de que pudiera convocarse la comisión de hacienda para debatir las enmiendas parciales ustedes no salieron de la cueva no salieron de la cueva para la negociación presupuestaria dijeron que no portazo y se acabó la historia esa es su hibernación así que también háganselo mirar

partimos de concepciones diferentes no de cómo se hace un presupuesto y cómo influye uno en un presupuesto y para qué utiliza

los votos necesarios para ocupar estos escaños porque al menos los socialistas vascos lo dijimos desde el inicio hemos firmado un pacto de gobierno y nuestros escaños serán herramientas útiles para solucionar y solventar los problemas de la ciudadanía vasca ustedes hacen los planteamientos y luego al final como me voy no me interesa no voto paso de esto de la democracia

los que estemos tirando del carro y eso no es propio de la izquierda o no debiera ser propio al menos de la izquierda en su concepto estará pero desde luego en el de los socialistas vascos

a nosotros al menos a los socialistas vascos nos son propios los principios de igualdad de solidaridad y de justicia social y si hay que ponerse a tirar del carro nos ponemos a ello pero no engañamos no venimos achacando a los demás acciones que no somos capaces de llevar a cabo nosotros mismos tuvimos

tuvimos responsabilidades para influir en las políticas de este país cuarenta años hace que los socialistas empezamos a realizar contribuciones

cuestiones en políticas públicas para mantener y reforzar servicios públicos queríamos que esas políticas públicas se ampliasen y se consolidasen en ese trabajo

nunca se les esperó nunca llegaron nunca han llegado a esos presupuestos a pactarlo jamás se han mojado

somos los demás los que tenemos que enfangarnos para sacar este país adelante y ustedes tienen la poca vergüenza de venir a decirnos a los demás que nosotros migramos qué migramos oiga salgan ya de la cueva de una vez

y entonces la izquierda podrá tener con ustedes algo que decir y algo que hacer mientras tanto mientras tan solo sean discursos con los socialistas vascos que euskal herria bildu no cuente

eskerrik asko casanova galdetzen duzu que por qué teniendo un cincuenta y uno por ciento de esta cámara que se

bueno yo lo he entendido así por qué no llegamos a más acuerdos a un acuerdo futuro de gobierno algo así no y ha hecho autocrítica porque bueno precisamente no habrán sido ustedes los que mejor hayan abonado ese terreno no voy a entrar ahí pero lo cierto es que a alfonso alonso en el canal veinticuatro horas una reflexión que me gustó dijo no hay que dejar que tu oponente

y vuestro problema es que el pnv es muy difícil de caricaturizar porque nosotros no nos

el que fue presidente de esta cámara juanjo pujana una vez no sé qué le preguntó no era militante era

nosotros qué somos de centro de centro izquierda centro derecha social demócratas y dijo

ya sabes con qué vehemencia habla él del cual se han ido desgajando

las más radicales pero seguimos siendo un partido de liberación nacional donde se reúne mucho tipo de gente entonces somos difíciles de caricaturizar y ese es un drama que tiene la izquierda abertzale en cuanto al drama que tiene el país es que la izquierda abertzale

en vitoria allí son en un principio de entrada abstención y aquí son de entrada el no

en la moncloa de que les homologuen como un partido sistémico en madrid sí sí suspiran por eso entusiasmados con que esquerra republicana les deje aparecer en la segunda fila de la foto

les debe convenir visto que no han entrado en el grupo siempre esperando a que el pnv se posicione

las diferencias pero la sociedad no espera a nadie y vamos a tener unos presupuestos acordados con elkarrekin podemos que van a ser favorables para

eta hortik aurrera erabakitzea negoziaziorik ez dela emango ba da hori ez traer el tarro de las esencias a una mesa de negociación presupuestaria y quedarse como siempre guardianes de las esencias el pnv seguirá aquí con una política humanista y posiblemente voy a terminar como he terminado todas las intenciones invitándoles

y que hagan un ejercicio político serio de madurez ya no es posible el próximo año

en el año dos mil once izquierda unida se refundaba

bajo el objetivo decíamos de luchar para transformar el país al servicio de la mayoría social trabajadora pensamos que no podemos avanzar en esos objetivos respaldando unos presupuestos como en años anteriores rechazamos que están al servicio

que no compartimos lo conocen ustedes perfectamente y que incluye un modelo fiscal que castiga a las y los trabajadores en beneficio de las rentas del capital y hemos denunciado muchas veces la hipocresía que para nosotros supone que el gobierno le diga a la gente que no se puede negociar fiscalidad y presupuestos cuando sí lo hizo con el partido popular

hemos votado por la devolución de estos presupuestos porque pensamos que las políticas del gobierno no han cambiado y nosotros tampoco hemos cambiado eskerrik asko

que escuchar la propuesta económica y política

nos reafirma en tratar por todos los medios de evitar

el sello del partido popular por eso y porque creemos sinceramente que las enmiendas presentadas por elkarrekin podemos por un lado dan respuesta

y por otro lado ponen algunas políticas en la buena senda para solucionar algunas de las cuestiones que se han señalado por los anteriores intervinientes educación con una mayor inversión en la escuela pública para garantizar que sea el instrumento que asegure la igualdad de oportunidades ponen los cuidados en el centro con medidas específicas

mejoran la calidad de los servicios públicos y la protección social de las familias

nuevos caminos para una transición energética y política de adaptación al cambio climático justas y hacen hincapié en la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra las violencias machistas

han obviado en su enmienda a la totalidad y es por esto que elkarrekin podemos facilita la tramitación de estos presupuestos

y para que euskadi se empiece a parecer más a la euskadi que soñamos y por la que luchamos nuestra voluntad transformadora nuestro proyecto de país alternativo nuestra visión de cómo hacer la transición ecológica o nuestras políticas feministas no se van a quedar solo en un bonito y apasionado discurso en el parlamento

y en este punto quisiera agradecer al consejero azpiazu y a su equipo el trabajo y la voluntad de trasladar al presupuesto cuestiones innovadoras y cuestiones novedosas

encima de la mesa ha sido una negociación compleja con muchas horas de trabajo invertidas que ha terminado en un buen acuerdo para que euskadi avance

no cabe duda de que estamos ante un momento clave en el que las decisiones de hoy perfilan la euskadi del futuro

cómo es más útil a la ciudadanía y será la propia ciudadanía quien valore la posición política de cada uno eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna